muchas gracias señora presidenta señorías señores miembros del gobierno eguerdi on señor lehendakari tiempos de crisis yo confieso que me ha dejado algo preocupado con la intervención de esta mañana le he visto además

como resignado a cumplir el deber de leer monótonamente la retahíla de planes y de acciones que le han reseñado los jefes de negociado y los responsables de los departamentos

podía haber sido bastante peor pero comprenderá que como yo no tengo la obligación de hacer esas referencias me

y haré abstracción de otras cuestiones que son muy importantes pero que parecen más bien de índole

la cosa señor lehendakari no está para muchas alegrías ha anunciado usted dos nuevas crisis posibles supongo que evitables una crisis económica y otra institucional ha manifestado

resolver otras dos crisis de no menor calado la crisis demográfica que tenemos los problemas

con reproches constantes a todos los demás de su responsabilidad y la de su partido en la crisis política que vive españa

a todos esos demagogos y populistas que ahora deplora

pero el tiempo demuestra que no han conseguido más peces que unos kilómetros de autopista y que en cambio han conseguido bloquear también la política en el país vasco

la gobernabilidad se ha convertido en un juguete que se puede romper que se utiliza para dinamitar puentes

aquí todo el mundo está ya en campaña permanente pero pedro sánchez cree que nos lleva ventaja porque empezó su campaña electoral el mismo día que se cerraron las urnas el resto ha sido una simulación no exenta de chalaneo

esto es lo que hay señor lehendakari a usted y al pnv un gobierno con podemos era la fórmula que más les interesaba llama la atención que su apuesta

políticas públicas consideraban de verdad que era el mejor gobierno para españa

o es que la única influencia que les importaba era la que podía tener su partido en ese posible gobierno

y su nerviosismo les delata es normal porque apenas les han llamado ni les han escrito

y volveremos a las urnas sin que ustedes hayan podido cobrar la factura por apoyar la moción de censura contra mariano rajoy primero

después está claro que fiar alguna expectativa al gobierno

pues ustedes qué han conseguido a cambio señor lehendakari nada

por tanto como yo ya le he dicho en numerosas ocasiones no es que el negocio haya sido malo para el pnv el problema es que el negocio está siendo muy malo para todos los vascos

que los acuerdos más importantes eran los que había firmado con el pp la renovación del concierto económico y el pacto fiscal que abrió la puerta de los presupuestos en un clima de estabilidad hoy se presenta este debate con los presupuestos prorrogados y con una producción legislativa que se resume en siete leyes aprobadas de un calendario de veintiocho

lo peor no es el escuálido resultado sino la indefinición que preside su manera de hacer política que busca no se sabe si contentar a todos o disgustarlos por igual

pensar que podían no negociar las leyes como si a los grupos de la oposición nos correspondiera una adhesión incondicional a sus políticas como

de una mayoría absoluta que les permitiera aplicarnos un rodillo

no se le ha visto con mucho ánimo de eso esta mañana ya reconoció recientemente que eso además no dependía tanto de usted como de factores externos

no por culpa de los demás considere usted la ley de aportaciones no son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ustedes actúan como si les bastara con estar

con contrastar con un gobierno de españa a la deriva desde hace más de un año como si fuera suficiente ambicionar ser los tuertos en el país de los ciegos

pero las consecuencias las arrostra el interés general de los vascos y del conjunto de los españoles

hoy ha anunciado que el próximo treinta de noviembre la comisión de expertos alumbrará el texto articulado del nuevo estatus vasco

y ha tenido el cuajo de hablar de consenso entre diferentes

no conviene confundir los buenos modales con una pretendida adhesión a sus planes este invento

y eh bildu que por cierto hoy ha preferido no mentar

la soberanía nacional y la unidad constitucional y proclamar la autodeterminación después durante meses

sometiendo a discusión generalidades que eludían siempre el núcleo de la cuestión

que además de experto es político en activo en el congreso de los diputados plantea esa propuesta a la que se ha referido usted y llama concierto político se lo voy a decir sin ambages esa propuesta

la hemos conocido desborda la constitución supone una deslealtad inaceptable de ser aprobada será rechazada por las cortes como ya pasó con el plan ibarretxe

de la propia sociedad vasca de efectos imprevisibles ustedes no pueden ignorarlo lo saben perfectamente

en esta ocasión además esgrime la disposición adicional primera de la constitución que manipulan de forma torticera tienen el atrevimiento de despojar de los derechos históricos a sus legítimos titulares que son los territorios forales esto es

y atribuírselos al pueblo vasco es el mayor ataque que ha sufrido la foralidad desde que franco suprimió los conciertos económicos de bizkaia y de gipuzkoa

es inconstitucional lo digo con más claridad el pueblo vasco quería un lugar a la comunidad autónoma de euskadi no tienen ni ha tenido nunca

pero además utilizar al mismo tiempo los derechos históricos para destruir la propia unidad constitucional y la soberanía nacional lleva a un conflicto

los derechos históricos de los territorios vascos no han sido nunca eso y no lo pueden ser antes son reconocimiento de la soberanía nacional

en nombre de la construcción de una nación vasca centralizada uniformadora y acaparadora del poder más allá de las propias leyes lo hemos dicho en esa comisión

hemos presentado nuestra advertencia de legalidad pero quiero pedírselo a usted encarecidamente

que nos aboca a un choque de trenes jamás aceptaremos su teoría de que la voluntad política que llama principio democrático está por encima de la ley que es el principio de legalidad ese nuevo status que anuncia liquida el estatuto de gernika la unidad de españa dinamita nuestro sistema foral

que con otra cosa es una irresponsabilidad señor urkullu jugar con un plan que es abiertamente ilegal y que no puede tener ni encaje constitucional ni recorrido institucional

el gran amago de reforma el banderín de enganche electoral de verdad piensan convertir

no lo encuentra temerario sabe usted que el estatuto concita el apoyo del más del ochenta por ciento de los vascos

den por muerto ese pacto contra la constitución que cerraron con eh bildu vienen tiempos complejos

cambiar de nombre las cosas no modifica su sustancia cada año llaman a este desafío de una manera distinta antes nación foral o estado confederal ahora concierto político pero viene a ser lo mismo y ustedes lo saben

esto nos anunciaba usted porque ha venido un poco agorero esta mañana ha afirmado que mantiene las previsiones de crecimiento para el próximo año pero ha manifestado a reglón seguido que no está en condiciones de garantizarlas en ese escenario incierto lo que menos necesitamos es una crisis institucional que ahuyente la confianza y las inversiones porque no todo es de color de rosa ni mucho menos

en alemania a la que ha hecho referencia la guerra comercial entre estados unidos y china o el brexit

en el mes de agosto registró el mayor incremento de paro

la tendencia fue similar en el país vasco tres mil parados más

si tiene usted la tentación y la ha tenido también esta mañana de presumir de ser una de las comunidades con menos paro de españa le aconsejo analizar con más profundidad los datos para descubrir

esos números de hecho la práctica totalidad del empleo que se creó el pasado año fue en el sector público se destruyó empleo en la industria creció el empleo de baja calidad

descendió el número de autónomos por encima de otras comunidades y expulsamos a jóvenes con formación más elevada ante la baja oferta de empleo cualificado por si fuera poco el país vasco se encuentra entre las siete comunidades que ofrecen las peores condiciones para trabajar con un porcentaje de parados de larga duración

y una brecha salarial que sigue estando por encima de la media nacional

un dos coma dos por ciento lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de casi el uno por ciento en los dos últimos años por la subida de los impuestos mientras el gasto corriente del gobierno vasco se dispara

y las ayudas a las familias se recortan pero afirma usted que estamos preparados para afrontar la crisis si llega y cómo señor lehendakari sin presupuestos sin haber aprovechado la recuperación para cometer ninguna de las reformas que necesitamos

señor urkullu tengo la sospecha de que ustedes en realidad

andan haciendo que buscan un socio que se los apoye eso es verdad pero esa ingenuidad de mantener las puertas abiertas a todos

es muy difícil acordar con quien no parece disponer de un proyecto claro para el país vasco sabe bien que no existe ninguna posibilidad de que este grupo comparta las mismas políticas que bildu o podemos porque nuestros proyectos no son compatibles

aunque a veces creo que son ustedes sinceros en la defensa

porque tampoco parece que compartan proyecto con su socio de gobierno

que buscan de manera preferente el acuerdo con el pp sobre todo usted

usted el único de su partido que quiere acordar conmigo entiendo que no es por amor debe ser por necesidad

porque salieron escaldados de la experiencia con bildu y porque podemos amaga mucho pero no acuerda nada

la sinceridad de sus intenciones de todos modos es analizar los gestos que han hecho ustedes para intentar ablandar nuestro corazón se los voy a recordar

a mí no y a mi partido tampoco tras las últimas elecciones municipales su máximo empeño aislar y excluir políticamente al pp allá donde han podido lo hicieron en navarra donde pactaron con bildu para impedir un gobierno de navarra suma no les importó nada el varapalo que les habían dado los navarros al gobierno de

hoy gobierna el partido socialista gracias al beneplácito de otegi tampoco tuvieron ningún reparo en pactar con bildu

que era el partido más votado en ambos municipios se ha dado cuenta usted de que su partido mantiene acuerdos con todos los partidos de la cámara excepto con el partido popular

socios de podemos en madrid por tanto sus gestos y la realidad política

a mi partido en el país vasco partido que les vale para proporcionar numéricamente la mayoría

que utilizan porque tiene sentido de la responsabilidad y lo voy a seguir teniendo pero que al mismo tiempo buscan eliminar del escenario político y del paisaje social

incumplen los compromisos acordados en el último pacto presupuestario de dos mil diecisiete entonces se asumió la rebaja del impuesto de sociedades pero se asumió también el compromiso de abordar en dos mil veinte una reforma del impuesto de la renta

durante la crisis ahora dicen que el dos mil veinte es para empezar a estudiarlo con lo cual no sabemos cuánto tiempo

el objetivo nuestro es dar más protagonismo a la gente un impulso a la sociedad

esto se ha hecho en el resto de españa se subieron los impuestos en el trece después se han bajado varias veces aquí no aquí nos dedicamos a engordar

no es un dato menor que en dos mil dieciocho se

en seiscientos sesenta millónes en comparación con dos mil trece y fíjese somos siete mil vascos menos y no hemos recuperado la tasa de ocupación que teníamos previa a la crisis

se está exprimiendo para no hacer ninguna política desde el gobierno y nosotros queremos que esas cosas cambien ya le he anunciado públicamente y haré en los próximos días procederemos a registrar en las juntas generales de los tres territorios

porque usted luego me dice yo no puedo hablar de estas cosas porque soy lehendakari

lo registraremos en sustitución en las juntas generales una propuesta de reforma fiscal para meter un revulsivo

nosotros pensamos que hay vida más allá del control permanente y de la intervención

y tenemos plena confianza en la sociedad vasca estamos firmemente convencidos de que esta tierra puede ser más dinámica y emprendedora si se le dan las herramientas que necesita

de que el dinero de los ciudadanos donde peor está es en sus propios bolsillos plantearemos la reforma para mejorar la renta disponible de las familias incrementar nuestro atractivo

ustedes ya me dirán cuál es su propuesta si quieren hacer alguna y si es posible alcanzar un punto de encuentro pero yo lo vuelvo a repetir sin reforma fiscal no haya acuerdo presupuestario posible

con esta propuesta que han colado por vía reglamentaria ustedes y sus socios del partido socialista de euskadi

que es verdad que son todos vascos esa medida al parecer no ha necesitado adicionales pero señor lehendakari no todos los ciudadanos vascos estamos en condiciones de jugar en el athletic por mucho que entrenemos

qué más quisieran la mayoría pero no pueden acceder a esas medidas

todos los meses que le supone un esfuerzo enorme llegar a fin de mes y ve que sus gastos crecen y sus ingresos menguan

se lo dije también en privado y quiero repetírselo hoy en público

pero el miedo de su gobierno y de su partido a perder poder le mantiene bloqueado

y deja correr el tiempo haciendo como que hacen mientras esas reformas se acomodan en el limbo

no puede ser mayor me pregunto cuánto tiempo más podemos soportar sin una estrategia seria para afrontar el reto demográfico sin abordar un cambio profundo en el sistema de protección social

solo tenemos uno coma ochenta y ocho trabajadores por cada pensionista dicen que hace falta dos coma cinco el país vasco languidece señor lehendakari

el déficit vasco en pensiones se conoció también el otro día llegó a cuatro mil millónes de euros el año pasado es el doble que hace siete años cuando usted asumió el cargo

somos el doble de dependientes de la solidaridad del resto de españa que cuando usted llegó y encima

la falta de voluntad de su gobierno para revertir esta situación es patente siguen sin dotarse una política integral de apoyo a las familias

esta mañana ha pedido usted un plazo hasta dos mil treinta para atenderlo ahí es nada once años más pero usted ya lleva siete no ayuda para nada

en vez de favorecer una inmigración para el empleo y la verdadera inserción

que condena a muchos de los que vienen a euskadi a la dependencia social indefinida

hay que cambiarlo veremos si una tramitación de la ley son capaces de plantear una estrategia en profundidad

para convertir a lanbide en un servicio de referencia y que efectivamente las personas que tienen dificultades

grupo coquetear en este tema con las posiciones de bildu tanto en la negociación presupuestaria que salió mal como en el proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes allí aprobaron una subida de salarios de los funcionarios y los conciertos educativos en un dos coma cinco

pues está siendo de un dos coma dos por ciento la financiación está aumentando

a pesar de recibir ayudas sociales y eso da cuenta de que el sistema

yo quiero ser exigente en la petición de más controles y creo que deberíamos coincidir yo creo que es posible desarrollar un nuevo modelo vinculado a la formación

social que los beneficiarios efectivamente puedan recibir programas presenciales de formación que ejerzan su corresponsabilidad y que se evalúe su aprovechamiento que de verdad se ocupen ustedes de la gente

y creo que tendrá que elegir y tendrá que decir con quién hace la reforma y si hacemos la reforma en serio y me parece que nuestra oposición

sensata y es una oposición centrada y no entenderé que

nuestro modelo educativo pues funciona peor que antes somos líderes en gasto por alumno pero tenemos un fracaso en los resultados académicos resultados mediocres

que empezó en dos mil cinco sin que el gobierno vasco haya sido capaz de frenarlo

están ustedes en los trabajos de elaborar la ley de educación

sus leyes se demoran siempre pero lejos de tranquilizar al sector educativo está sembrando la discordia entre los diferentes agentes

en la estructura y en la financiación de la educación nosotros promovimos el incremento en la financiación de los conciertos educativos

que acoge prácticamente a la mitad del alumnado vasco pero que recibe el treinta y seis por ciento de la financiación hay mucho malestar

para este año esto preocupa profundamente a las familias y causa perjuicio

mire el desequilibrio en el trato de ambas redes la obsesión con el euskera todo eso contribuye a anular la libertad de elección en el país vasco hoy ha hablado usted de equidad pero yo le digo igualar a todos a una calidad mediocre no es equidad adoctrinar no es equidad

equidad es conseguir una calidad real que les abra oportunidades de futuro señor lehendakari tuvo usted que retirar porque era de su competencia el programa educativo herenegun

del sectarismo ideológico que a veces se trata de imponer en la enseñanza vasca era un intento de fortalecer la teoría del conflicto y de equiparar a víctimas con verdugos con la agravante en esta ocasión de estar dirigida a menores de edad

como el verdadero enemigo de esta tierra debería ser la esencia para la construcción de la convivencia en el país vasco necesitamos consolidar nuestro futuro sobre cimientos éticos claros sin embargo la respuesta de su gobierno muchas veces es

contemporizadora y buenista con quienes hoy se sientan todavía en este parlamento

autocrítica sobre su complicidad en la limpieza ideológica

toda su vida a través del asesinato el acoso y la extorsión todavía no se ha producido eso hoy ha pedido en este pleno una posición consensuada de todos los grupos en este tema dice necesitamos un consenso

consenso sobre qué para qué ha servido entonces la ponencia de memoria y convivencia no recuerda que nosotros dijimos para que esa ponencia pueda ponerse en marcha para poder participar también nosotros claro que hace falta ese consenso pero sobre un suelo ético y una base moral la necesidad de que esta gente condene de una vez

no está garantizada en todos los rincones del país vasco ni para todas las personas

tan importante como esta quedan espacios de odio

este año se han producido más de cincuenta homenajes y actos de culto al terrorismo en el país vasco y en navarra el año pasado fueron ciento noventa y dos ciento noventa y dos homenajes la presentación como héroes de quienes fueron criminales asesinaban a sus semejantes

también para la juventud creo que es un asunto muy preocupante sabe usted cuál es la realidad de la gente que no se siente nacionalista la imposibilidad de expresarlo en todos esos espacios que están comidos por el odio

o que va a haber libertad en el país vasco hasta que cualquier persona en cualquier lugar del país vasco pueda ir si quiere con una bandera española y no le pase nada no habrá libertad o qué es la libertad

nacionalistas para poder convivir en paz eso no puede ser

son derechos humanos y porque además ese ejemplo que se ofrece a los jóvenes y esa manera en que se le obliga a vivir a la sociedad vasca no garantiza

en el futuro voy a ir terminando yo estoy comprometido a fortalecer una alternativa de ambición para el país vasco quiero que se rearme económica social y éticamente esta sociedad

hay que apostar para eso por un país vasco abierto en el que se creen oportunidades que quiera ser motor de transformación económica y social para el resto de españa no que quiera ser una pesadilla un quebradero de cabeza y un elemento de discordia con el resto de españa

pero para eso hay que confiar en las personas porque ese es el activo que tenemos en el país vasco solo las personas

y hay que liberalizar también las políticas en ese sentido orientado a que las personas puedan desarrollar su iniciativa para qué sirve la política señor lehendakari para qué sirve yo no le pregunto todos los días usted se lo tiene que preguntar desde luego no es para

que pueda aplastar en las elecciones o que va invadiendo los espacios de libertad de la gente

no es para quitarle protagonismo a la gente ni a la sociedad ni para favorecer esa pérdida de protagonismo social ante un partido político

que nos previene de tener algún tipo de pensamiento crítico nunca no es para eso la política

yo manifestaré con coraje y con energía mis posiciones políticas si son distintas que las suyas pero no me verá a mí cavando trincheras

con las manos atadas como sociedad para afrontar los retos de futuro la política tiene que servir para transformar la sociedad el problema

es que su desempeño en estos años el de su gobierno y el de su partido ha destilado

llevamos dos legislaturas sin saber muy bien cuál era el propósito para el país vasco más allá de ocupar todos los espacios de poder por lo demás no hay ni ruido ni reformas ni leyes ni rumbo estamos en los últimos coletazos de una legislatura fracasada y usted lo sabe mejor que nadie

es que usted quería pasar hoy de puntillas que no tiene nada más que ofrecer y que no quiere hablar ya más de nada usted

y qué es lo que pretende hacer tendrá la oportunidad esta tarde mire y todo esto no ocurre porque mi grupo no haya tenido disposición a colaborar

ahora nuestra colaboración siempre ha tenido condiciones pedía valentía pedía también respeto en fin quería también poder tener una interlocución con alguien que tuviera realmente capacidad

su socio de gobierno eso lo estamos viendo también últimamente todos los días

con la vacuidad de las palabras con la ausencia de los hechos no tiene marcha atrás pero le diré que yo no me resigno ni me resignaré nunca a no ofrecer y promover un proyecto alternativo que de verdad

de un futuro de éxito muchas gracias eskerrik asko eskerrik asko

arratsalde on lehendakari jauna sailburuok legebiltzarkideok gonbidatuak lagunak el grupo socialista viene a este pleno con el ánimo de rendir cuentas no ante los grupos sino ante la sociedad porque adquirimos un compromiso con ella y queremos hablar

del que permite desplegar el autogobierno el que mediante acuerdos entre diferentes nos permite seguir construyendo la euskadi social y de progreso en la que siempre hemos estado los socialistas un recordatorio más que oportuno

a un mes de celebrar el cuarenta aniversario del estatuto yo quiero hablar de esas cosas que ese estatuto nos ha permitido ir construyendo que nos lo permite hoy también hablaré de lo que falta por supuesto pero sobre todo recordaré que esas políticas

son posibles gracias al mejor pacto de convivencia que hemos sabido hacer y son posibles porque lo hemos sabido desarrollar con una voluntad compartida entre diferentes

cuando alguien lo dio por muerto hace dos décadas cuando alguien decidió cambiar la fructífera senda del entendimiento entre diferentes por la frustrante vía del entendimiento entre nacionalistas este año se cumplen diez desde que los socialistas rescatamos ese estatuto del cajón olvidado de ajuria enea recuperamos su uso intensivo porque nos daba herramientas para hacer frente a la brutal crisis que heredamos

se ha revitalizado así que mi grupo llega a este pleno de política general con la satisfacción de ese doble aniversario del que fuimos protagonistas el de su nacimiento el del nacimiento del estatuto y el de su rescate eta autogobernuari buruz hitz egin nahi dugu bai egin dugunari buruz

aplicarnos todos ese y cuál es la capacidad que nos dio la ciudadanía cuántos escaños tenemos cada cual y cómo queremos usarlos para orientar las políticas

en este parlamento así que si hay alguien que tiene tentaciones de usar este año para revolver vaya por delante que los socialistas lo vamos a utilizar para resolver

un contexto internacional lleno de riesgos e incertidumbres que han sembrado líderes temerarios líderes aupados al poder

a todo lo demás que están poniendo en claro peligro la convivencia la economía y los pilares del sistema de bienestar lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos a un entorno tan peligroso pero la mejor forma de hacerle frente desde euskadi es fortaleciendo los derechos y las libertades

y fortaleciendo nuestro tejido productivo es lo que estamos haciendo y necesitamos aliados los necesitamos en el resto de europa y los necesitamos en el resto de españa donde se ha expandido el virus sectario euskaldunei

hauteskundeetara y ahí los socialistas vascos volveremos a reivindicar lo que más le conviene a euskadi un gobierno liderado por pedro sánchez porque se ha comprobado el compromiso del presidente sánchez con esta tierra con el progreso y la convivencia lo sabe no hay ninguna amenaza recentralizadora por parte del estado la hay por parte de algunos agentes en el estado y no precisamente de los socialistas eso está demostrado por eso nos conviene un gobierno socialista y cuando eso ha ocurrido en el pasado a los vascos nos ha ido mejor así que el grupo socialista espera

podamos volver a contar con un gobierno de españa aliado con las preocupaciones de nuestros vecinos pero las citas electorales no pueden paralizar al gobierno vasco no lo ha hecho esta primavera pasada y no lo debe hacer este otoño y de lo que hemos hecho

el lehendakari en relación a la convocatoria electoral este sí es el último debate de política general antes de que todos nos presentemos ante la ciudadanía vasca

que está en el primer folio del acuerdo que suscribimos el empleo generar las oportunidades para la creación de puestos de trabajo en el ámbito privado y consolidar el empleo público la primera vez que participé en una sesión como esta fue hace cinco años y expresé mi mayor preocupación la mejora de la economía que exhibía el gobierno de entonces no conseguía reducir el paro en mi primer minuto de intervención hablé de las ciento setenta y cuatro mil personas que no conseguían encontrar una oportunidad

siguen en esa situación para el grupo socialista esta sigue siendo una preocupación máxima pero hemos hecho una cosa muy importante generar las condiciones para crear cincuenta y ocho mil nuevas oportunidades no es consuelo

no lo es pero ya lo he dicho ni oasis ni apocalipsis hoy hay más gente con empleo que contribuye y que cotiza a la seguridad social

personas de aquí de toda la vida quienes vienen de otros lugares de españa quienes llegan de otros países para construir euskadi juntos con iguales derechos e iguales obligaciones

a quienes estigmatizan a los que llegan de fuera y mujeres

somos nosotras las que estamos tirando del carro de las afiliaciones de la seguridad social todavía no en las condiciones a las que aspiramos es verdad y me referiré a ello cuando hablemos de la mesa de diálogo social pero quiero destacar esto porque fue

esenciales que adquirió mi partido con la ciudadanía en las últimas elecciones autonómicas fue uno de los principales empeños que pusimos cuando negociamos el acuerdo de gobernabilidad que las mujeres queríamos salir del lugar de la compasión y la protección para garantizar nuestra plena participación en todos los ámbitos sociales que la exigencia de igualdad así lo requería pero que sobre todo euskadi necesita incorporar

todo el talento de la mitad de su población que somos las mujeres y lo estamos haciendo posible entre todos lo estamos haciendo posible en lo que le corresponde al gobierno hemos creado un escenario de estabilidad que favorece la contratación para seguir creciendo así hemos desmentido a los agoreros que anunciaron el caos con medidas sociales de tanto calado como la subida del salario mínimo esa es la vía que se apruebe donde se debe el salario mínimo y la mejora de los ingresos

declaraciones voluntaristas para implantar sueldos y pensiones para quedar bien cada jueves se puede seguir engañando a los trabajadores y pensionistas en precario

cuando gobierna en algún sitio pero también se puede que es lo que hacemos los socialistas avanzar en donde realmente es posible hacerlo en acordar con quien quiere hacerlo y decir la verdad a la ciudadanía aquí teníamos la posibilidad de generar nuevos nichos de empleo podíamos hacer que el turismo fuera un sector residual en nuestro tejido económico o convertirlo en una industria moderna y sostenible podíamos hacer que las comarcas más desfavorecidas encontraran

podíamos hacer de todos nuestros atractivos como país un motor económico real consolidado de calidad y sostenible

el de confrontar a quienes estamos con los que nos quieren conocer y es lo que hemos hecho esta legislatura con el turismo consolidar una actividad que ha venido para quedarse

y que supone ya el seis por ciento de nuestra riqueza y que tiene todavía recorrido y con el comercio

de nuestra riqueza o la ambiciosa propuesta para proteger a los consumidores en este mundo de riesgos consumidores somos todos nos protege a todos todo esto es posible porque como decía el gobierno vasco con su obligación política la de entender el valor de la estabilidad de pactar lo que nos une y administrar las diferencias propias de una sociedad plural como la nuestra esa es la mejor inversión

para afrontar los retos que tenemos por delante una triple inversión inversión en política en acuerdos y en acciones concretas inversión en el apoyo a nuestro tejido productivo

necesitan herramientas para seguir creando riqueza y empleo para orientar su internacionalización en un entorno global y para fomentar su innovación inversión en cohesión en el sistema público que

para el crecimiento económico ese está siendo nuestro esfuerzo

un catálogo sobre todo lo que nos falta y estoy segura de que incluso compartiríamos gran parte del análisis pero los socialistas hemos entendido que era lo importante por eso

una hoja de oportunidades de más derechos de puertas abiertas a la emancipación de nuestros jóvenes con un trabajo y con una vivienda que puedan pagar

los socialistas fuimos capaces de liderar la conquista de un nuevo derecho el del acceso a la vivienda y en esta nos hemos comprometido a desarrollarlo se ve

lo hacemos con la construcción de nuevas viviendas con la captación de deshabitadas y con las ayudas directas queremos que la vivienda accesible sea también una seña de identidad de euskadi con nombres propios bizigune

que se está mejorando para poder llegar a más jóvenes porque la juventud es uno de los colectivos a los que el departamento de vivienda atiende de forma preferente por eso va a disponer de un cupo de acceso prioritario en los pisos de alquiler por eso también trabajamos en una ley de juventud como ya hicimos hace dos legislaturas por cierto que fue bloqueada por razones ajenas a su contenido es lo que tiene la oposición

en sostenibilidad social tenemos más recursos gracias a una fiscalidad más progresiva y los aprovechamos para sanear las cuentas para estar mejor preparados ante nuevos riesgos y para la inversión social que ya he citado lan iruzurrari gogo biziz aurre egin diogu beharrezkoa zen

lan iruzurra porque creemos

y sus representantes porque creemos en quienes tienen iniciativa empresarial y quieren sacarla adelante en las mejores condiciones de competitividad el camino es ese el encuentro no la confrontación como estrategia y es que a las mujeres que siguen padeciendo la brecha salarial no les soluciona nada

lo que les soluciona es la vigilancia exhaustiva de la legislación en contra de cualquier discriminación la lucha contra los contratos fraudulentos que están muy feminizados la creación de unidades de igualdad en las inspecciones de trabajo la exigencia de cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas por eso es una buena noticia

para abordar desde la raíz las causas de la desigualdad económica y de nuevo aquí podremos entrar al catálogo de lo que falta pero estamos sembrando el camino para poner coto a uno de los déficits más importantes que tenemos como democracia la discriminación

de ser mujer en ese camino este año se ha dado un gran paso que además tenía un respaldo previo de esta cámara el que garantiza la corresponsabilidad parental

el derecho por igual de padres y madres a atender a sus hijos va a ser un freno a quienes lo utilizan como excusa para discriminar laboralmente a las mujeres pero teníamos tarea hecha desde el gobierno como consejera empecé a fomentar estas medidas

porque estas cuestiones que tanto nos preocupan hoy formaron parte de una reflexión estratégica de aquel gobierno

todos los escenarios de futuro ante una realidad demográfica

lo que se está haciendo ahora es profundizar en las medidas que nos permitan adecuarnos a esa realidad una realidad en la que entre otras cosas hay que proteger

si quieren ser madres o no en esa defensa tenemos que seguir porque vemos que todo lo que habíamos ido ganando en este terreno hoy se pretende destruir desde otras

hoy hay parlamentos y gobierno que frivolizan con nuestros derechos

esta cámara que representa a la ciudadanía vasca debe renovar el compromiso con la igualdad y renovamos también nuestro compromiso con mejorar la protección legal y de asistencia

agredidas es ahí donde hemos querido poner el foco con el nuevo decreto de justicia gratuita al que deben acudir tantas mujeres nos queda más nos queda mejorar la protección de las víctimas de violencia de género que fue una de las aportaciones socialistas al acuerdo de gobernabilidad

con amplio consenso y sobre todo con un mensaje claro las instituciones vascas

no tenemos duda de qué lado estamos estamos del lado de las mujeres y también nos falta algo más en esta legislatura y que no queremos que termine sin rematarlo

anuncié que los socialistas nos comprometíamos en la elaboración de una ley vasca de memoria histórica lo hice desde la convicción de mi partido y lo hice porque como consejera me correspondió a empezar a desarrollar

pero es que además es un reto democrático vemos otros gobiernos autonómicos recién surgidos que se han apresurado a colocar una nueva y pesada losa sobre quienes fueron fusilados perseguidos y esclavizados durante el franquismo esta ley vasca que complete la estatal se la debemos

se la debemos para que recuperen la dignidad que les quisieron robar hay que cerrar con memoria democrática la herida en la que siguen hurgando quienes desprecian a esas víctimas en esto los socialistas somos claros

con todos los totalitarismos hay que saber la verdad y hay que deslegitimar cualquier razón que en algún momento alguien haya esgrimido para matar secuestrar marginar torturar y perseguir a otro ser humano sin excepciones

y eta acabó todavía hay quienes excusan a franco y todavía hay quienes excusan

repudiamos el franquismo y el terrorismo y no podemos admitir que haya quienes todavía en esta cámara relativicen una sola forma de vulneración de derechos

lehenago ere ez nunca más y nunca antes nadie debió ser desposeído de su dignidad humana para ser un elemento a destruir por ningún objetivo político por eso el grupo socialista mantiene su propuesta de un pacto social

queremos un rearme moral de la sociedad sobre una idea básica

ni ahora ni en el futuro vamos a encontrar ninguna razón política que justifique el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos aquí se acabó con vidas aquí se secuestraron muchas vidas porque se quería acabar con la pluralidad

hemos hecho valer la euskadi diversa la euskadi en la que todos podamos defender aquello que queramos la euskadi donde pactamos unas reglas para que todos podamos caber

esa riqueza que tanto sufrimiento ha costado preservar tiene que ser el motor nuevo pacto que queramos construir los socialistas nos hemos implicado en cada momento de la historia en conseguir los acuerdos que han hecho posible que llegáramos hasta hoy y nos vamos a implicar a fondo en todos los que pudiera a ver mañana todos debiéramos de tener claro que cada intento por excluir a una parte de la sociedad su forma de sentirse ha fracasado y que todos los intentos por incluir a toda la sociedad

fracasaron estella uno y estella dos en los años treinta del siglo pasado y en la primera década de este

los pactos integradores de los años treinta y de los setenta cualquier cosa que quiera remplazar la experiencia de mayor éxito de nuestra historia

deberá sostenerse sobre la pluralidad y la legalidad cualquier intento de romper lo que tanto ha costado coser cualquier idea de categoría ciudadana en función del sentimiento estará abocado

eta alde batera utzi lan guztia pikutara bidali zezaketenak porque si hacemos este viaje que sea para lograr algo mejor más integrador

no vamos a subirnos en ningún tren que vaya a descarrilar y sobre todo que se lleve por el barranco todo lo que hemos logrado

señor lehendakari usted ha vuelto a traer aquí su propuesta la suya y la de su partido la del concierto político sabe que no es la nuestra pero sobre todo

unos objetivos que compartimos que podemos compartir en gran medida pero por la vía inadecuada los socialistas también queremos un autogobierno con garantías claro que sí pero no lo vamos a conseguir con un modelo confederal como el que usted propone por eso defendemos una reforma constitucional que otros no han querido pero olvídense por favor del modelo confederal y unamos fuerzas para mejorar el sistema actual

logremos objetivos compartidos por caminos viables y efectivos porque el próximo veinticinco de octubre

cuarenta años desde que los vascos por primera vez pudimos votar cómo queríamos ejercer nuestro autogobierno se cumplen cuarenta años desde que abrimos las puertas al periodo de mayor prosperidad que ni siquiera el propio terrorismo pudo abatir abrimos las puertas a que todos incluso quienes rechazaron aquel acuerdo

no es con la salud que perdemos la cita suele ser con la celebración de haber llegado como el mayor tesoro eso es lo que desde luego los socialistas vamos a volver a celebrar

hemos hecho crecer euskadi y vamos a seguir usando ese preciado instrumento que es el estatuto esperamos contar con todos en la ley de economía social

pero tenemos leyes atascadas que afectan a la regeneración democrática como la del sector público y la de transparencia buscamos el acuerdo ahí y en la ley que blinde nuestra protección social la que haga que nadie que lo necesite se quede sin su derecho que nadie que no lo necesite se quede con un euro que no le corresponde y a la que haga que menos gente la vaya necesitando cada día hoy hay diez mil familias menos que dependen de esta protección que hace cinco años pero hay casi cincuenta y cinco mil que lo siguen haciendo

este es nuestro objetivo conseguir que haya menos personas que se acojan porque mejoramos las pensiones y porque mejoramos las condiciones salariales de los trabajadores

todos los grupos pueden hacer sus aportaciones y cuando digo todos digo todos

ha empezado el trámite y ya están sobrando los eslóganes hay que trabajarla y queremos que sea con el máximo consenso y no por simples mayorías

pero con un mismo objetivo queremos una revolución normativa

del que ya nadie se puede esconder la crisis climática y la imprescindible transición ecológica es cuestión de salud pero también es una cuestión de igualdad porque si no lo hacemos bien quienes más saldrán perjudicados serán los menos protegidos en este último año hemos conseguido ser referencia internacional con la conferencia change the change

queremos transformar la realidad por eso a partir de las conclusiones de esa conferencia el departamento de medio ambiente impulsó un acuerdo

trabajaremos ese acuerdo y lo haremos también con los presupuestos abiertos a todo yo no voy a especular con las intenciones de nadie

porque esa la aclaro yo estamos dispuestos a sentarnos y a acordar una vez más mirando la propuesta que tengamos delante y no las urnas

sincera en la que puedan tener cabida las aportaciones de todos porque eso de las presuntas coincidencias entre la oposición para bloquear y su nula capacidad para ser alternativa ya va teniendo un par de respuestas electorales y parece que no sale mucho a cuenta

también para paralizar la acción de gobierno aunque no lo hayan conseguido pero luego hay que rendir cuentas ante la ciudadanía y explicarle para qué se ha utilizado su voto

ni cuestionaré la estrategia que cada grupo quiera practicar en esta cámara si algo conozco bien porque como consejera me tocó sufrirlo es una oposición inmisericorde

fuimos capaces de diseñar las transformaciones de nuestro sistema sanitario educativo en innovación en regeneración democrática y transparencia de las administraciones todo eso que ahora mismo y que por la acción socialista primero en la oposición y luego en el gobierno

yo no interpretó alianzas ni explícitas ni implícitas ustedes pactan lo hacemos nosotros y no nos escondemos y nos parece muy positivo que eso sea así

lo que no aceptamos es que quienes tienen esas prácticas de pactos cruzados esgriman vetos cruzados para seguir adelante con las propuestas legislativas y presupuestarias

akordatzea dela pero nos queda más por hacer tenemos que recibir del gobierno un proyecto de ley de educación es una gran asignatura pendiente la vigente ley de la escuela pública vasca que comenzó josé ramón recalde y culminó fernando buesa ha sido un ejemplo de cómo construir

un modelo que ha garantizado la estabilidad en el sistema educativo a dos generaciones durante más de un cuarto de siglo la puesta al día de nuestro sistema educativo debe seguir teniendo como ejes la escuela pública y el equilibrio social las aulas son el primer escenario donde nuestros jóvenes se juegan la igualdad del futuro

en igualdad de oportunidades a otros estudios superiores y al mercado laboral

por eso es poco explicable que las aulas se conviertan en elemento de confrontación y el alumnado se convierta en rehén de otras estrategias los socialistas volvemos a reivindicar hoy el derecho de los trabajadores a mejorar sus condiciones laborales y el derecho de las familias a que sus hijos reciban una enseñanza a la altura de sus necesidades

y al derecho a la educación que deben preservar los centros educativos diálogo y acuerdo también para el derecho a la salud y el derecho a contar con los mejores profesionales con todas las garantías de acceso a sus plazas con todas las garantías para que la ciudadanía cuente con la mejor atención en nuestros ambulatorios y hospitales

y una sanidad para atender todas las necesidades así quiero agradecer expresamente a colectivos como naizen el impulso de iniciativas que hacen avanzar dentro de la diversidad está claro que esta cámara ha sido receptiva a una demanda justa con las personas transexuales también es un reto dar una respuesta adecuada a la reforma integral del servicio público audiovisual fue una de las cuestiones que los socialistas pusimos en agenda e incluimos como compromiso de legislatura el debate se ha hecho

con participación de expertos de ciudadanía y de los profesionales de e i te be trabajaremos unas bases de amplio consenso que consigan que la nueva e i te be sea eficiente

estas son algunas de las cuestiones que tenemos en la agenda inmediata sin pensar en elecciones los socialistas no vamos a engañar a nadie ni vamos a practicar el bienquedismo

los socialistas vamos a dedicar el tiempo que nos queda a resolver hemos empleado estos años la agenda del gobierno con la agenda de la ciudadanía ahora la estamos alineando con la agenda internacional con la de las naciones unidas con los objetivos de desarrollo sostenible ese es el nuevo lenguaje universal con el que nos tenemos que entender todos por encima de fronteras y banderas

sabremos que quedarán muchas cosas por trabajar pero sabremos también

va a dejar una euskadi mejor es tiempo de rematar lo que hemos empezado es el tiempo de sentar unas bases que permitan preparar el futuro y es tiempo y hora de que esta cámara

que merece la ciudadanía que nos ha votado todos los grupos tenemos esa oportunidad y cuenten con que el partido socialista estará comprometido con ese objetivo eskerrik asko

ondoren suspertzen ziren bitartean la crisis y las políticas que se vienen ejecutando han dado paso en nuestra opinión a un cambio dramático en la sociedad vasca un cambio dramático hasta el punto de haber normalizado aquello de lo que por primera vez en décadas nuestros hijos van a vivir peor que nosotros

nosotros no nos resignamos a aceptar esta realidad una realidad que no ha reconocido usted en su discurso de esta mañana los guiños hechos

las palabras han de contrastarse con los hechos las políticas realizadas estos años por su gobierno no solo no han combatido las consecuencias de esa crisis

y más desigual la mayoría ha sido obligada a sufrir un empeoramiento de sus condiciones de vida para garantizar el aumento de las tasas de beneficio del capital y el cómodo modo de vida de quienes sustentan el poder económico el modelo de este gobierno

en la lógica del mercado capitalista una lógica incompatible con modelos basados en una justa distribución de la riqueza pensamos que a este gobierno no le preocupa lo más mínimo que durante toda la legislatura las rentas de los capitalistas en euskadi hayan aumentado groseramente su diferencia respecto a las rentas de los trabajadores y sobre todo de las

de hecho la política fiscal aplicada en euskadi producto de un acuerdo a tres bandas entre el partido nacionalista vasco el partido socialista y el partido popular ha ayudado a incrementar

han perdido diez puntos de poder adquisitivo en la última década en medio de una competición por bajar los impuestos a empresas con beneficios y el último capítulo sobre fiscalidad el conocido

luego se dirá que no hay dinero para las desmesuradas peticiones presupuestarias en servicios públicos que hacen aquellos locos comunistas de elkarrekin podemos pero por supuesto ustedes no quieren ni oír hablar de un acuerdo con elkarrekin podemos en materia fiscal han venido rechazando hablar con nosotros en una cuestión tan importante como esta con diferentes excusas así hemos visto cómo acordaban la política fiscal con el partido popular en el marco de negociaciones presupuestarias

se trata de un ejercicio de hipocresía no es la primera vez que se lo digo y de doble vara de medir en nuestra opinión por una única razón pensamos que su modelo

que yo lo digo en esta cámara el modelo del gobierno vasco se basa también en la entrega a empresas privadas de la gestión de los servicios públicos

a la entrega de lo público a manos de contratistas cuyo único objetivo

y de la explotación indecente de sus trabajadores estamos viendo la multitud de conflictos laborales que hay en estos sectores la extensión del empleo precario

esta realidad está machacando a la sociedad vasca de manera especial a la juventud

a esta situación el gobierno se ha limitado a hacer propaganda y a revisar algunos miles de contratos

su actuación y la del conjunto de su gobierno siempre ha mirado más por los intereses de la gran patronal que por los intereses de la clase trabajadora usted reconoció como un error de su gobierno incluso asumió la responsabilidad personal por haber firmado un acuerdo en materia de empleo con la patronal sin ni siquiera haber hablado con ningún sindicado a espaldas de los sindicados y nosotros reconocemos el valor de quien admite errores señor urkullu créame

rectificó y reconoció aquel error y nosotros lo reconocemos pero pensamos también que aquel capítulo evidenció esto que décimos evidenció claramente hacia dónde miran ustedes evidenció con quiénes cuentan y con quiénes no cuentan ustedes a la hora de hacer políticas públicas pensamos que no cuentan con las y los trabajadores

porque pensamos que nuestras políticas y nuestros planteamientos sí miran o intentan mirar con determinación y con fuerza a esa mayoría trabajadora y social que es la parte más vulnerable
de nuestra sociedad que es una sociedad injusta eskerrik asko eskerrik asko

el estado que refleja la repetición de las elecciones generales casi un año de gobierno en funciones es malo para euskadi y es malo para el estado especialmente

crecemos a menor ritmo que el conjunto del estado y que la industria lo hace por debajo de las previsiones euskadi ha perdido más

y todo parece indicar que la destrucción de empleo se generalizará ya hay

siguen subiendo los contratos temporales y siguen bajando los contratos indefinidos pero es que además del desempleo el gran problema estructural

que junto a malas condiciones laborales son las razones principales de la conflictividad laboral que viene viviendo euskadi en los últimos años

de las huelgas del metal las grandes movilizaciones laborales

mayoritariamente subcontratadas que prestan servicios públicos educación concertada atención primaria limpieza de comisarías

o tabakalera creemos firmemente que en la lucha contra la precariedad las instituciones y las administraciones públicas deberían ser un ejemplo y una fuente de empleos dignos izan ere lehendakari jauna aipatu

heltzea la semana pasada pudimos leer mucho mucho sobre las diferencias de rentas que existen en euskadi es evidente que hay personas a las que las cosas no les van bien los índices de bienestar y pobreza son peores

y el número de personas atendidas por los servicios de protección social es mayor que en el peor momento de la crisis qué estamos haciendo mal lehendakari

y sin embargo esto no evita que cada vez a más personas en euskadi les cueste llegar a fin de mes o tengan una calidad de vida digna

del propio modelo porque también somos el territorio que más gasta en dependencia pero tenemos a trece mil personas esperando para alguna prestación o servicio

que son mayoritariamente cuidadas por sus hijas madres hermanas

esta sobrecarga empuja a las mujeres a la precariedad laboral la parcialidad en euskadi es casi en su totalidad femenina y mayoritariamente involuntaria en dos mil dieciocho el treinta y dos por ciento de las mujeres trabajaban a tiempo parcial frente al veintiséis por ciento de dos mil diez sí en medio de la crisis

y por otra parte son el setenta y cinco por ciento de las personas que trabajan sin contrato a lo que hay que sumarle el veinticuatro por ciento de la brecha salarial y las desigualdades señor lehendakari son el caldo de cultivo de las violencias en dos mil dieciocho hubo

doscientos veinticuatro mujeres más que en dos mil diecisiete y trescientos sesenta y cinco mujeres denunciaron agresiones sexuales fuera del ámbito familiar

estas cifras son inasumibles y es evidente que los pasos gracias a la presión y a la exigencia social se quedan muy cortos hay que ir a medidas de mayor calado y a un mayor compromiso presupuestario

pero si hay un grupo social que ha empeorado su situación y sus expectativas debido a la crisis

es la juventud con una tasa de desempleo que ronda el veinte por ciento y una edad de emancipación media de treinta años las personas jóvenes no encuentran su lugar en los retos de futuro que les presentan hoy

y un apunte más que no puede faltar en este diagnóstico el altísimo precio de los alquileres en euskadi está convirtiendo el acceso a la vivienda

en un lujo para las rentas más bajas y en algunos municipios en particular por otra parte usted ha leído una larga lista de planes de acciones

que en su día tuvo en la economía vasca la crisis industrial que vive euskadi desde hace una década se ha cronificado

hacia los nuevos retos globales y buscar nichos donde garantizar sus sostenibilidad

sobre todo proveedores fabricantes de componentes que son la mayoría en el sector en euskadi y la petroquímica afrontando tarde su adaptación a la movilidad a la nueva movilidad es cierto que su gobierno ha suscrito el acuerdo del clima de parís

hasta el punto que somos uno de los territorios europeos que más contribuyen al cambio climático con unas emisiones per cápita por encima de la media española y por encima de la media europea

han sido o ineficaces o inexistentes eta diagnostiko hori abiapuntu

en primer lugar permítame decirle que además de ser un error estratégico euskadi pierde una gran oportunidad al separar y considerar como un reto aislado la cuestión energética ecológica

de nuestra economía a la lucha contra el cambio climático sea el núcleo de un programa transformador de gran calado que sirva

debe de ser un catalizador para relocalizar la producción y el consumo de todo tipo de productos desde alimento hasta energía tiene que ayudar

hacia sectores de alto valor añadido y sobre todo deben generar empleos de calidad

y las empresas vascas son más vulnerables a sufrir las consecuencias de una nueva crisis es porque no se han tomado medidas estructurales las políticas económicas

y sociales de hace veinte años ya no sirven para construir el futuro y este es el planteamiento que vamos a defender cuando hablemos de cambio climático y de transición ecológica

desigualdad contaminación y no crea oportunidades para las personas jóvenes es obvio que lo mejor que podemos hacer por este país es construir otro justo limpio y de futuro gure ustez gainera izugarri

supone asegurar la igualdad de oportunidades y la misma calidad en el acceso a los servicios públicos de todas las personas con independencia del lugar

la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las violencias machistas han sido una prioridad desde el nacimiento de nuestro espacio político y creo que nadie duda que hemos sido vanguardia en este parlamento en cuanto a propuesta y enfoques políticos pero al igual que el reto ecológico la igualdad no puede encapsularse en un área todos los departamentos

deben revisar sus políticas desde una visión feminista

con medidas y presupuesto de la erradicación de las violencias machistas y la transformación del modelo de organización social para que las vidas de las personas estén en el centro

porque la llamada crisis de los cuidados no se soluciona con ayudas económicas puntuales los cuidados deben ser un derecho

o trabajar y esto enlaza directamente con el reto demográfico que usted plantea de nuevo hay dos maneras de afrontarlo o parcheando con medidas estrella

el déficit de servicios públicos relacionados con la infancia y con las personas dependientes baina desberdintasunarekin ere badu zerikusirik

para hacer frente a los retos que nos enfrentamos euskadi necesita de la creatividad de la innovación

por ello no entendemos diseñar la euskadi dos mil treinta sin tener en cuenta las dificultades de las personas jóvenes y por último

llevamos tiempo trabajando y reivindicando la importancia que usted hoy le ha dado en su discurso las migraciones es sin duda un tema de país

en el que buscamos poder mejorar aportando sinceramente fuera de intereses partidistas fuera de intereses mediáticos es imprescindible que las personas migrantes

ni discriminación esto pasa por definir un modelo vasco de acogida con herramientas inclusivas y para ello solicitamos que su gobierno

para que desde el ejercicio de nuestro autogobierno euskadi pueda afrontar este reto con todas las herramientas a su alcance bien

de la situación de euskadi el horizonte que elkarrekin podemos plantea para hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos

en materia de memoria y convivencia usted nos propone avanzar en el reconocimiento a las víctimas y realizar una reflexión crítica hacia el pasado violento con una mención explícita al papel jugado por eta aceptamos ese reto el de asentar una convivencia plenamente democrática

y sólida en derechos humanos deslegitimando toda forma de violencia y toda conculcación de esos derechos diciendo que todo acto violento fue injusto

y trabajando para que todas las víctimas tengan el mismo derecho a la verdad a la justicia al reconocimiento y a la reparación también las víctimas de abusos policiales y de sufrimiento queremos reparar y reconocer de una vez por todas

y asegurarles un trato humanitario en todo esto podemos encontrarlo señor lehendakari a través de acuerdos amplios y plurales también en materia de autogobierno seguimos convencidos de que es posible un nuevo estatuto avanzado en lo social que sea una herramienta fundamental para afrontar los retos a los que nos enfrentamos como sociedad

elkarrekin podemos solo estará en acuerdos que cohesionen

que sumen y que resuelvan problemas y no que dividan

en ese sentido queremos poner también en valor desde aquí el trabajo que está realizando el llamado grupo de expertos akordioak bilatu

nuestro objetivo prioritario para los próximos meses es muy claro definir un escudo económico y social que prepare a euskadi ante la crisis económica que se avecina y la inestabilidad general de nuestro entorno porque el escudo que teníamos hasta ahora

para elkarrekin podemos este debe de ser uno de los elementos centrales del fin de la legislatura trabajar en medidas concretas que nos permitan hacer frente a la crisis económica protegiendo a las familias apoyando a las empresas

a la vez que impulsamos una adaptación solvente y duradera de la economía vasca

ha hecho una valoración demasiado optimista del lugar donde estamos quizá debería reconocer que euskadi parte de una situación peor que la de hace diez años y a partir de ahí

para proteger y preparar euskadi para la crisis económica que se avecina sobre todo a las familias y a las personas que pueden perder su empleo este es el contexto

se puede hacer mucho para proteger a euskadi de una crisis global usted tendrá que demostrar si tiene la capacidad y si tiene la voluntad

vivimos en un mundo en una europa en la que la amenaza de la extrema derecha y la xenofobia y el recorte de derechos

y sabemos que este auge está históricamente relacionado con la pérdida de poder de la ciudadanía

pues poder es bienestar es igualdad para todas y para todos bienestar es crecer crecer cuidando radicalmente el medio ambiente y ya va siendo muy tarde bienestar es identidad cultural cuidados protección

educación servicios sociales es repartir la riqueza no conformarse con gestionar la pobreza

que españa es para euskal herria una hipoteca pues eso mismo y en propuestas audaces vemos a un gobierno vasco aunque hoy en algunos momentos me han parecido dos y con las espadas un poco sacadas y algunos en plena campaña electoral pero yo me dirijo a usted señor lehendakari un gobierno vasco que continúa hablando de un tren y de unas pocas transferencias y olvidando otras y le dije el año pasado que seguiríamos en las mismas si seguían cuarenta años reclamando lo mismo

las voces que nos anuncian la llegada de una nueva recesión o sea yo creo que una crisis son cada vez más

y esta situación generalizada en españa bueno

sumidos en una crisis política de la que son incapaces de salir y a la que son incapaces de dar solución cuatro meses después de las elecciones qué tenemos

y su gobierno y usted mismo lehendakari se muestra muy preocupado por la situación española preocupados

a los problemas de este país que haya un gobierno estable en españa gernikako estatutuari dagokionez ere salbuespenezko

poniéndole encima de la mesa desde hace tres años que el estado español está sumido en una grave involución

que nos viene encima que tenemos las manos atadas porque no tenemos soberanía con lo cual usted nos ha dejado más incertidumbres

usted nos dice y las estadísticas dicen que la economía crece y el paro baja pero es ya evidente que eso no garantiza el bienestar se instala la precariedad y sube el riesgo de pobreza en araba bizkaia y gipuzkoa desde mil novecientos ochenta y seis

nunca había habido tanta gente en la comunidad autónoma vasca con riesgo de

aumenta el riesgo y aumenta la incertidumbre porque cada vez son más las personas que no llegan a cubrir los gastos básicos alcanzan a máximos históricos los impagos

a gastos imprevistos las situaciones de ausencia de bienestar experimentan un incremento espectacular y alcanzan casi a cuatrocientos ochenta y cinco mil personas

vive muy bien el que vive o la que vive muy bien pero tener cerca de medio millón de personas que no alcanzan las cotas mínimas de bienestar supone que estamos en una sociedad que cada vez es más desigual se ha incrementado la desigualdad de mano de su gobierno

dos mil ocho el treinta y cuatro por ciento de todos los casos de pobreza real se concentraba en hogares encabezados por mujeres han pasado diez años y

y se acordará usted que uno de los compromisos de su gobierno era reducir la pobreza en un veinte por ciento sus políticas de cohesión social

y en las prioridades que nos marcamos en el debate presupuestario del año pasado y seguimos comprometidas también este año insisto seguimos comprometidas también este año

con los que mantiene contacto su gobierno hablan de un empeoramiento muy preocupante de la situación y probablemente tengamos que hacer un diagnóstico compartido pero lo que sí vemos en este momento es que ante el chaparrón que se nos avecina

estamos ante una situación de excepcionalidad y creo que debemos buscar respuestas excepcionales y yo le reto a que lo hagamos

pues si hay voluntad nosotras y nosotros en euskal herria bildu estamos dispuestos a comprometernos con la gobernabilidad de este país y eso incluye los presupuestos hagámoslo posible

ustedes piden pactos de estado para construir un tren pues vamos a hacer pactos pactos de estado aquí en araba bizkaia y gipuzkoa que no es el estado que desearíamos pero

eta iruditzen zait galtzen ari garela galtzen ari gara estamos perdiendo perdemos hasta lo que tenemos como por ejemplo con euskaltel que tuvo

de una empresa extranjera después de sucesivos pelotazos que contaron con el visto bueno del gobierno vasco

y hablo de fiscalidad porque es uno de los principales mecanismos para la redistribución de la riqueza pero la política fiscal que tenemos gracias al pacto pnv pse pp es una política fiscal regresiva y además es injusta y se ha demostrado ineficaz

de las administraciones vascas y que lo que nos ha traído son recortes y desigualdad euskal herria energia berriztagarrietan erabat

y le puedo decir lo mismo sobre la investigación pero este gobierno a veces parece haberse sumado al modelo de españa

y sigue sin apostar por la investigación desde luego estamos muy por debajo de la media

por debajo de china o de corea del sur estamos perdiendo talento en ocasiones auténticas eminencias científicas por racanería o falta de altura de miras maltratar laboralmente y económicamente a las personas más preparadas de esta sociedad y

y claro se van y eso a lo mejor no pasará factura en las próximas elecciones pero desde luego pasará factura a este país

aurkeztu duzue una ope de doscientos quince plazas pero lo que usted no ha dicho es que son para cubrir plazas de médicos que ya están que no son más médicos

baina uste dut politika integralak behar direla no se van a pagar las pensiones porque nazcan más niños y niñas que cuando empiecen a trabajar cobren sueldos de ochocientos euros y coticen una miseria o si se pagan se pagarán también pues unas pensiones de miseria eta zu gaur etorri zara

porque todos los retos que ha planteado todas las políticas que pudieran emprenderse desde aquí

oztopoa ere etxean sartu zenuen usted decidió pactar con el pse sabiendo que impediría este camino lo ha dicho muy claro hoy la señora mendia

de llevar al país al borde de la quiebra y otras cosas que les dijeron supongo que se acordará hemos pasado años oyendo que

es la muleta del partido nacionalista vasco pero fíjese que se me está poniendo la duda de si no es al revés usted es la muleta del psoe un socio aparentemente cómodo aquí

amarrados en madrid y esto sin olvidar jamás al partido popular kontua da urkullu jauna

si hay tentaciones o no centralizadoras o recentralizadoras sí sí hay tentaciones recentralizadoras y están ahí pero también

o la oportunidad de que las naciones sin estado encuentren el estatus que les corresponda también existe esa oportunidad en un debate de esa naturaleza por lo tanto es un tema político

la interdependencia entre la generación y distribución de la riqueza hori da kontzeptua eta hori da hazkunde inklusibo baten bila zertarako objetivo eliminar desigualdades

un imperativo ético moral o político que también de justicia social sino porque es un factor de crecimiento económico eliminar desigualdades

necesita de la anterior pero se debe a la que le sigue y el concepto de solidaridad

o lo aplicamos también desde esa ética en dimensión social o lo demás vamos a dejar a quienes nos sigan un sistema que sí

solvente aparentemente en cuanto a materialización de derechos pero no en su mantenimiento a futuro sostenimiento a futuro por lo tanto las decisiones que se deban adoptar

la legislatura pasada se ha avanzado mucho en políticas sociales el objetivo es afianzar y mejorar miguel laparra ha hecho un gran trabajo

cuantías máximas cuantías máximas para una persona para una persona en el reino unido trescientos treinta

alemania cuatrocientos veinticuatro francia quinientos sesenta euskadi seiscientos sesenta y siete y navarra seiscientos veintitrés

quiero decir con esto que hay cuando menos una convergencia en la planificación y en el diseño de las políticas sociales que se está haciendo desde el gobierno vasco y desde el gobierno de navarra desde el primer gobierno presidido por uxue barkos y ahora presidido por chivite

como posibilidad de que tengamos zonas de encuentro porque si voy a la fiscalidad señor hernández mire en el programa a partir de la página cincuenta el programa de navarra donde se habla del gasto eficiente de modelo de gestión lucha contra el fraude fiscalidad para la actividad económica impuesto de sociedades beneficios fiscales deducciones

hay desacuerdos pactados es verdad hay una adenda de esos acuerdos pactados pero la filosofía

no es incompatible entonces la pregunta es bueno hay otra

mayor autonomía en los tributos convenidos y salvaguardar mira esto no tenemos en el concierto económico

hemen zergatik ez zergatik yo no estoy mirando a ver dónde gobierna podemos

marchando a una comunidad no no a navarra y no es que gobierne podemos gobernamos juntos

está en el sesenta y ocho por ciento de lo que es la media europea entonces unión europea a quince después cuando ha ido a veintiocho la media ha bajado

de los fondos estructurales de europa fondos de cohesión españa para que ustedes me hablen del déficit de la seguridad social españa ha recibido ciento sesenta y ocho mil millónes y ahora

con respecto a la media no llega a la media euskadi recibió de esos

de ser con respecto a europa la media del ochenta y seis al ciento veintiuno hori da gauzak

millón de millónes euskadik

que es una previsión estatutaria dieciocho punto dos y transitoria quinta es una competencia

de romper el carácter unitario que no es lo mismo que caja única ni los lazos o el respeto al principio de solidaridad

por supuesto porque es previsión estatutaria por el alto porcentaje de cotizantes con bases máximas de cotización por el tejido empresarial

permitiría la articulación permitiría la articulación de un sistema propio

baina esaten du hay que hacer tres cosas reconocer disculparse y compartir aitortu

porque el texto articulado del nuevo estatus se corresponderá necesariamente con las bases y principios aprobados

y los potenciales acuerdos que deriven de la reflexión del dictamen de los expertos pues serán sometidos también a criterio de la ponencia yo

legislatura pasada con trabajos inconclusos pero que después arrancamos

y es posible que estemos a caballo de otra legislatura yo creo que esas bases y principios tienen esa vocación de

de la presencia de las formaciones políticas respectivas en qué grado o nivel apoyen esas bases o esos principios por lo tanto yo sin entrar

cuando nos ha hecho la disquisición de los derechos históricos y aparecen en el estatuto y no aparece

que no estaba discutiendo con una compañera de partido pero parecía parecía

no supone la renuncia de los derechos históricos que pudieran corresponderle al pueblo vasco a ninguno dice usted

esa tradición histórica paccionada con los requerimientos democráticos eso que usted tanto denosta que es el principio democrático

puede surgir un acuerdo puede surgir un acuerdo pero bueno no voy a insistir en el tema

si queremos avanzar la era peneuvera se ha de acabar eso

nos ha referido larraitz si queremos avanzar la era peneuvera se ha de acabar pareado eta arnaldok yo os vuelvo a insistir

podemos once psoe nueve bildu dieciocho somos mayoría en el parlamento vasco y en el conjunto del país y esas son las cuentas que hay que hacer a futuro

ese es el planteamiento además repetido machaconamente

la nueva teoría no de la izquierda independentista pues nosotros no sé si somos imprescindibles o necesarios por abertzales porque ahora ya como

entonces dice pues no querrán acuerdo en temas socioeconómicos

por parte de un parlamentario de la izquierda abertzale de aralar que hablaba

si los números que hay que hacer de aquí en adelante son otros pues entretenimiento el justo eta ikusi

señor alonso usted ha desplegado hoy toda una retahíla de reproches y críticas

también pero no solamente me preocupa lo que ha dicho

además la distorsión con respecto a muchas de las cuestiones que usted ha criticado por ejemplo las causas las razones también para la moción de censura

las iniciativas que otros partidos políticos promovían para proceder a la moción de censura las posibilidades que el señor rajoy tuvo también ante sí en la moción de censura me preocupa la distorsión también en relación a lo que es la reforma fiscal la interpretación que usted ha hecho también de lo que es el compromiso de cara a la evaluación del año dos mil veinte de los resultados de la reforma fiscal

la interpretación que ha hecho del concierto político pero quizás luego pueda extenderme en esta cuestión me preocupa lo que ha dicho pero me preocupa el tono las constantes líneas rojas que va poniendo en el camino de manera sibilina

no facilitarlos acuerdos para autojustificarse en definitiva de su autoexclusión me pregunta usted

precisamente para acordar soluciones y no para crear problemas ha reflejado usted una situación catastrofista de la situación económica y social de euskadi es la misma canción de siempre la realidad sin embargo es la contraria yo no me voy a detener en todos los indicadores que podía mostrar ni a usted ni a otros parlamentarios o portavoces de grupos parlamentarios

muchas de las cuestiones que ha modo de indicadores podíamos

euskadi ha mejorado en todos los parámetros en estos últimos cinco años y está mejor preparada señor alonso esto es un logro colectivo no solo del gobierno vasco

y es un logro colectivo lo que me pregunto es por qué en lugar de poner palos en las ruedas no se suma usted a esta tarea ahora

cuando la referencia hace cinco años podría también incluirles a ustedes la convivencia se está consolidando en la sociedad vasca

tenemos proposiciones mociones aprobadas que derivan también esta cuestión a la ponencia de memoria de la que ustedes están ausentes señora alonso

lo hemos hecho juntos en este parlamento no presente esta cuestión la de los homenajes de eta como una realidad que nos divide señor alonso porque sabe usted que no es verdad

entendemos como derechos humanos y el pluralismo también el diálogo participe en la ponencia de memoria de este parlamento

ese suelo ético que hace ya tres legislaturas en este parlamento también se aprobó

hablando de diálogo dele una oportunidad al grupo de expertos dele una oportunidad al grupo de expertos y contribuya a escuchar el acuerdo que pueda ser alcanzado y a ensanchar dicho acuerdo

señora mendia esta mañana he realizado un balance de un gobierno que funciona y del que nos sentimos orgullosos de haberlo compartido y de tenerlo también en este momento con el partido socialista de euskadi en muchas instituciones de la comunidad autónoma del país vasco

para dar respuesta a las necesidades de las personas especialmente el empleo como usted ha reflejado esta es nuestra prioridad también avanzar en cohesión social

así lo vamos a seguir haciendo y en la ponencia de autogobierno ya que ha hecho la referencia también al concierto político en la ponencia de autogobierno compartimos el objetivo de alcanzar un acuerdo para profundizar en nuestro autogobierno que significa más bienestar reitero

con el resultado en el resultado del trabajo de grupos de expertos

yo me he expresado en muchas ocasiones no solamente en el día de hoy en muchas ocasiones anteriores y qué diferencia hay de interpretar concierto económico que tienen un sistema bilateral de garantías a un concierto político

bilateral de garantías elkarrekin podemosi

ustedes están gobernando varias comunidades autónomas y como he dicho en algunos plenos también en los que esta cuestión se ha suscitado

una medida que haya aplicado y se pueda aplicar aquí

ya desde hace años nos hablan de desigualdad social en euskadi no niego que tengamos que seguir mejorando pero como he dicho esta mañana euskadi se encuentra entre los países punteros de europa en igualdad social por encima de países como holanda dinamarca suecia o alemania

sino todo lo que en estas últimas semanas se está publicando también por parte de observatorios y de institutos

queda mucho camino por recorrer sí y en ese camino podemos encontrarnos tengo esa ilusión de que también con ustedes podamos encontrarnos

señor martínez podemos encontrarnos en temas también de memoria como usted ha dicho de autogobierno

ante las incertidumbres que vivimos lo cito tal y como lo ha hecho usted usted sabe que con realismo y voluntad podemos hacer mucho

yo así lo he escuchado si no es correcto rectifico

diré que creo que no solo es posible sino que es deseable y le digo lo mismo que al partido popular al señor alonso dejemos trabajar al grupo de expertos

el concierto político como una oportunidad para ensanchar el autogobierno y favorecer un nuevo pacto el modelo de concierto económico es

por qué no extender ese modelo a las reformas y a las relaciones políticas es una oportunidad egindako aipamen orokorrei

jaurlaritza un elemento importante que se ha mencionado son los presupuestos

creo que hoy está condicionando también este debate en algunas intervenciones aprobar los presupuestos es invertir en estabilidad las puertas están abiertas

lo responsable elaborar un proyecto realista ajustado y centrado en las necesidades del país he presentado las diez prioridades que contendrá el presupuesto y seguiremos primando la inversión la innovación y el equilibrio social

abrir un diálogo centrado en los contenidos presupuestarios el gobierno quiere presupuestos y va a trabajar para tener presupuestos el escenario electoral en españa no va a detener nuestro proceso la disposición del gobierno vasco al diálogo y al acuerdo presupuestario es total eusko

no son un obstáculo al contrario son también las prioridades del gobierno señor martínez

como la transición ecológica construir un país socialmente y territorialmente equilibrado e igualitario trabajar contra la precariedad en el empleo hay grandes coincidencias en paz y convivencia migración o cooperación para el desarrollo

las he citado entre las prioridades en todo caso hay espacio para la negociación solo pedimos realismo y responsabilidad ante la delicada situación que vivimos

y señor alonso también para usted las puertas reitero están abiertas las circunstancias políticas en el estado señor alonso han cambiado

cuando fuimos capaces de acordar los presupuestos dos mil dieciocho y le invito a analizar las prioridades y partidas presupuestarias con una actitud abierta sin introducir condicionantes extrapresupuestarios como en el ejercicio anterior que le coloquen a priori al margen de la negociación somos conscientes de las incertidumbres económicas el reto es mantener una actitud responsable y contribuir a generar más empleo de calidad tenemos problemas sí ahora bien el primer trimestre del año dos mil trece euskadi estaba en recesión y llevamos

y mantenemos las previsiones anunciadas para este año y el próximo mantenemos las previsiones de todo lo que nuestro contexto sucede pero mantenemos las previsiones para este año y el próximo dos coma tres por ciento para este año y dos por ciento para el año que viene hace seis años septiembre dos mil trece había ochocientos sesenta y seis mil personas cotizando a la seguridad social

personas más trabajando y cotizando y avanzamos empleo a empleo cuántas veces me habrán escuchado a mí decir empleo a empleo y hablar de tendencia y hablar de dientes de sierra de picos y valles

nos puede afectar afirmo que estamos preparados y que unir fuerzas es la actitud responsable

nada de autocomplacencia he hablado de autoexigencia y no oculto los problemas al contrario los sigo de cerca reitero lo dicho esta mañana los problemas y necesidades

dificultades de empresas y sectores de actividad que se ha mencionado también por el señor hernández niveles de pobreza aún elevados que también se han mencionado en diversas intervenciones dificultades de integración social y laboral de las personas migrantes que también se ha mencionado

creo que se quería decir también innovación reforzar la atención primaria revertir los bajos índices de natalidad que también se ha mencionado brecha salarial en comarcas que han sufrido la crisis económica o la lacra de la violencia machista que también se ha mencionado

son problemas que conocemos de cerca que van a seguir centrando nuestra atención y nos queda mucho camino por recorrer sí y ante ello autoexigencia empezando por uno mismo

aipamen zehatz batzuk lehen kritika gobernuaren jarrerari buruzkoa da se habla de falta de liderazgo de

fracasada lo ha dicho el señor alonso en su intervención niego la mayor euskadi está mucho mejor que al comienzo de la legislatura

de la acción de gobierno déficit cero paro en el diez por ciento tenemos cien puntos sobre cien en transparencia internacional este año financial times sitúa a euskadi como destino atractivo para la inversión extranjera

sino por la unión europea y euskadi ocupa el primer puesto en el estado y es uno de los primeros de europa y se consigue estos sin hacer nada yo

apuesto por la responsabilidad y seriedad en la acción de gobierno

mi compromiso es la colaboración y el trabajo en común nosotros vamos a seguir defendiendo el interés de euskadi yo quiero lo mejor para euskadi lo mejor y pongo todo mi empeño también en las políticas sectoriales para ello euskadi es hoy nuestra garantía de futuro tenemos política industrial servicios públicos de calidad política social

euskadi tiene futuro y le sugiero que se sumen a este futuro colectivo se ha criticado por lo tanto la falta de acción del gobierno este último curso

encontrará por ejemplo las sesenta y uno actuaciones más relevantes del mes de julio sesenta y uno del mes de julio le voy a citar solo una docena

nuevo programa hazinnova para incentivar la innovación no tecnológica en las pequeñas empresas

proyectos de ley de conservación del patrimonio natural y administración ambiental presentación en acciones unidas de los bonos sostenibles euskadi conclusión del tramo guipuzcoano de la y vasca aprobación de las directrices de ordenación territorial

proyecto de ampliación y reforma del museo de bellas artes de bilbao plan de cultura dos mil diecinueve dos mil veintidós informe de víctimas mortales durante la guerra civil y el franquismo reunión con los tres diputados generales para compartir retos y estrategias de futuro como país he citado solo las doce actuaciones más destacadas del pasado mes julio

mejorar la calidad del empleo es un objetivo de país no solo del gobierno

hemos institucionalizado la mesa de diálogo social es el marco para mejorar la calidad del empleo para enfrentar la brecha salarial o incrementar las inspecciones para evitar el fraude

es una referencia y no porque lo diga yo me atrevo a utilizar también palabras publicadas el treinta y uno de julio en una entrevista al

no hay ningún modelo equiparable en el estado es un referente en europa no aceptaremos ningún ataque al modelo vasco de cohesión social ahora bien como todo sistema

y hemos hecho una propuesta concreta a este parlamento una propuesta que además ha sido solicitada por diversos grupos parlamentarios que no fuera tomada en consideración o que no se planteara en este parlamento dejándolo ad calendas graecas

nuestro objetivo es garantizar la adecuada utilización de las ayudas sociales para que lleguen a las personas que más lo necesitan estamos potenciando los mecanismos de inspección y control para evitar

países europeos con menor desigualdad la pobreza grave en euskadi es del cinco coma uno por ciento y la media europea es del seis por ciento

las personas en situación de riesgo de pobreza grave cuentan con la garantía del sistema vasco de protección social no solo del gobierno de todas las instituciones públicas

con el tercer sector haciendo referencia a los perceptores de la renta de garantía de ingresos por ejemplo

un medio de comunicación reflejaba el menor número de perceptores o solicitantes de las ayudas de renta de garantía de ingresos algo tendrá que ver con lo que es la cohesión social que estamos trabajando e intentando alcanzar

es un dato de la asociación estatal de directores y gerentes en servicios sociales la unión europea ha publicado el estudio sobre cohesión social en el periodo dos mil catorce a dos mil dieciocho de un total

doscientos ochenta y uno regiones europeas hay treinta y ocho que han mejorado notablemente en cohesión social solo hay tres en el estado y una es euskadi y euskadi

en europa está en los puestos de cabeza migraziorako gizarte hitzarmena elkarrekin podemosek eta baita alderdi popularrak

erantzun humanitarioa emateko konpromisoa eskatzen dugu eta eskaintzen dugu es una propuesta para el consenso en positivo sin extremismos

desde el acuerdo sin confrontación una propuesta que conecta con el espíritu solidario y abierto de nuestro pueblo estamos trabajando para que obtenga un respaldo político institucional y social pleno se han citado las pensiones

renta de garantía de ingresos para complementar las pensiones ayudas contra la pobreza energética ayudas de emergencia social prestación complementaria de vivienda compensación al copago

y defendemos la garantía del sistema público de pensiones de hecho reclamamos la gestión del régimen económico señor alonso

como una prioridad de nuestro programa incluido en el estatuto de autonomía

invito a que lo hagamos juntos las pensiones probablemente también además de la situación que afecta al conjunto del estado español en lo que se refiere a las pensiones

si se gestionan aquí reconozco el desequilibrio del sistema entre cotizantes y gasto de pensiones en el conjunto del estado señor alonso

no particular de euskadi el pacto de toledo ha sido el marco de trabajo y espacio para el consenso

la viabilidad del sistema algún grupo parlamentario con representación también en el congreso de los diputados o algunos grupos parlamentarios

el acuerdo sobre las conclusiones del pacto de toledo en primavera de este año en el congreso de los diputados gazteriaren arazoak aipatu egin dira

bide asko dugu egiteko baina egungo egoera hobeagoa da se dice que por lo que he escuchado también a elkarrekin podemos eh bildu

las universidades estas últimas semanas o la formación profesional en relación a lo que es la contratación o la empleabilidad

de los estudios de formación profesional ahí están pero

realizado por el observatorio vasco de la juventud desde el año dos mil catorce la emigración de personas jóvenes por ejemplo ha tenido un descenso lento pero continuado en dos mil diecisiete según el eustat en euskadi la salida de personas jóvenes entre dieciocho y treinta y cuatro años fue de once mil quinientos seis en dos mil diecisiete

saldo positivo por ejemplo de seis mil ciento treinta y cuatro jóvenes entre las principales

becas prácticas en el extranjero nuevas experiencias un cincuenta y tres por ciento búsqueda de trabajo un cuarenta y siete por ciento

desde el gobierno somos conscientes de esta situación y estamos actuando con programas para la vinculación

siempre desde la consideración que una experiencia práctica y vital en el extranjero no necesariamente es negativa en un mundo cada vez más global yo creo que muchas y muchos de ustedes han estado también en las aperturas de curso en las tres universidades vascas y cómo en esas aperturas de curso también se han hecho balances

también en relación con los estudiantes vascos en el extranjero y se dice con orgullo laugarren kritika ekonomiaren eta enpresen zailtasunak

empresas en dificultades y zonas desfavorecidas somos conscientes del impacto de la crisis en zonas desfavorecidas especialmente la margen izquierda la zona minera

hemos aprobado el plan para las zonas de actuación preferente tal y como solicitó este parlamento contempla una respuesta integral en materia de reactivación económica vivienda y generación de oportunidades de empleo elkarrekin podemos también ha mencionado el sector de la automoción

desde nuestras competencias estamos respondiendo plan de industria cuatro punto cero

acuerdos para impulsar la innovación o la formación dual o el apoyo a la financiación

se ha planteado también el parón de la actividad y el consumo el decrecimiento el estancamiento miren a pesar de las dificultades

crece en euskadi hace seis años era

y este año estará por encima del uno por ciento somos conscientes de la incertidumbre económica mundial y euskadi no es una isla vamos a seguir trabajando para que el sector industria sea un motor de nuestra economía y su peso alcance el veinticinco por ciento en el año dos mil veinte nos encontramos en el veinticuatro coma dos por ciento muy por encima de la unión europea

las cifras de exportaciones alcanzan récord histórico en dos mil diecinueve este año por tercer año consecutivo esperamos volver a superar

se ha planteado por parte de eh bildu investigación investigación que vinculo también con innovación y estamos mejor que hace dos años pero es cierto por ejemplo en innovación

hemos comprometido un incremento anual del cinco por ciento en los presupuestos

tenemos que reforzar la inversión pública pero sobre todo la privada y aquella que afecta especialmente

estamos dinamizando el conjunto del sistema científico tecnológico y empresarial del país vasco con la mirada puesta en el año dos mil treinta

este año la inversión lo he dicho esta mañana ha crecido un catorce por ciento el último ejemplo es el compromiso con las inversiones sostenibles con cien millónes de euros son inversiones en infraestructuras educativas sanitarias sociales o medioambientales

de la federación para la defensa de la sanidad pública del estado en atención primaria que se ha mencionado

y muchas están ya en marcha hemos presentado una nueva oferta pública de empleo con doscientos quince plazas lo razonable creo

para responder a las necesidades que se plantean y que queremos resolver

izango da sobre el conflicto en parte de la red concertada mencionados también por el partido popular también por parte de eh bildu

aparte de la red concertada que tiene el conflicto medidas por ejemplo incremento salarial aprobado en febrero tanto para los docentes de la red pública como de la concertada reflejada en la propuesta de conciertos aprobada en consejo de gobierno hace dos semanas

planteamiento de recolocación de las y los trabajadores ante la previsible disminución de aulas como efecto del descenso de la tasa de natalidad

pedimos preservar el objetivo central de la continuidad en la educación no es necesario recurrir a la huelga cuando hay cauces para resolver los conflictos desde el diálogo y el acuerdo

señor alonso ha mencionado el programa herenegun y se ha puesto en duda dicho programa y yo pongo en valor el trabajo realizado los antecedentes

la voluntad de abordar este proyecto desde el máximo consenso posible y contando con el aval de las personas profesionales en educación estamos trabajando y ustedes lo saben bien también en lo que es las correcciones necesarias a hacer aquello que quizás no explicamos suficientemente bien

y vamos a contractar el proyecto piloto evaluarlo y seguir mejorando

el reto de la demografía es fundamental y no estamos avanzando lo suficiente tenemos un acuerdo institucional

no ha quedado ninguna solicitud de ayuda para las familias que no haya sido atendida no es suficiente y es crucial

lo he planteado como uno de los desafíos en el horizonte dos mil treinta en la transformación demográfico social que debemos acometer en positivo iruzurra

en los tribunales y en este sentido no voy a hacer ninguna otra observación sobre algo que ya escribí en el periódico de mayor tirada en el territorio histórico

a modo de artículo pueden recurrir a la hemeroteca

euskadi no es una isla lo he dicho en un sinfín de ocasiones no es una isla las personas pueden incurrir en actuaciones irregulares y cometer delitos

en euskadi no se ha dado ningún tipo de cobertura a los casos que se han producido

el mío personal es mantener el listón de la exigencia ética en el nivel más alto sobre la ope

vuelvo a decirlo estamos poniendo todos los medios con toda diligencia y transparencia para culminar la oferta pública de empleo con plenas garantías de igualdad de oportunidades este es el objetivo fundamental

oferta pública de empleo merecen nuestras disculpas y sobre todo nuestro compromiso para garantizar la igualdad de oportunidades hemos ofrecido una información completa y transparente tanto a los grupos parlamentarios como al ararteko y a la comisión de seguimiento de la oferta pública de empleo osakidetza ha remitido a la fiscalía toda la documentación que le ha sido solicitada

tenemos una sanidad con los más altos estándares que es patrimonio colectivo

espero además que las fuerzas parlamentarias avancen en la ponencia de memoria y convivencia

consenso para compartir una mirada crítica al pasado del terrorismo y la violencia eh bildu sinceramente debe realizar una revisión autocrítica desde una posición ética no desde una posición táctica

no se vayan por las ramas matar estuvo mal y punto autogobernua aurrena

lehentasunezkoa da espainiako gobernuak egutegi eta plan bat onartu egin du el sistema político e institucional vasco está anclado en nuestros derechos históricos señor alonso es singular primero respeto lo digo

para quienes se quieren hacer defensores del constitucionalismo recuerdo los derechos históricos están recogidos en la constitución y reconocidos por el tribunal constitucional

que se sumen voces acreditadas del partido popular esta negación significa

entre la sociedad vasca y el estado en relación a la ponencia de autogobierno el día treinta de noviembre reitero el grupo de trabajo anunció para esa fecha

por parte de las personas expertas que integran dicho grupo de trabajo que culminarían sus trabajos apelo a mantener la aspiración de ensanchar el acuerdo

necesitamos acuerdos de amplio respaldo para fortalecernos como nación el proyecto de autogobierno tiene que representar un avance importante

afianzando el poder contenido con los mecanismos de garantías suficientes legebiltzar honetan lan metodologia bat adostu dugu

los diversos grupos parlamentarios por lo tanto una oportunidad a la misma no es una vía unilateral

e insisto se está haciendo un trabajo para tejer acuerdos atendiendo a la metodología pactada por este parlamento yo defiendo la vía vasca la que llevamos ejerciendo décadas la vía progresiva que ha dado resultados progresivos reitero nuevamente una mención a los derechos históricos señor alonso quiero recordar que en relación a lo que es el autogobierno

la vía foral que el grupo parlamentario del partido nacionalista vasco planteó en el año mil novecientos setenta y siete a debate en el congreso de los diputados y que luego dio pie

de la constitución y su interpretación en todo caso yo sí quiero recordarle que la derecha española se quedó fuera del pacto estatutario hace cuarenta años que hoy

en el gobierno y cero reuniones de la comisión mixta de transferencias

a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la delegación del gobierno español aquí en euskadi siete años y cero reuniones de la comisión mixta de transferencias y le recuerdo señor alonso que hace un año usted negó en este debate en este mismo debate que el estatuto estuviese incumplido

este país tendrá un nuevo pacto político y estamos a tiempo de aportar de sumar de ensanchar un acuerdo interno más sólido y profundo no se queden atrás participen y sumen y sumen tomando en consideración los acuerdos de esta cámara los acuerdos de esta cámara también en relación al incumplimiento del estatuto de autonomía de gernika por otra parte

pretende el debilitamiento del sistema institucional vasco esa es la interpretación que yo hago de lo que he leído con respecto a lo que fue la convención del partido popular del país vasco

me da la impresión de que lo que se pretende es precisamente el debilitamiento del sistema institucional vasco su propuesta es

reducir las aportaciones al gobierno vasco por lo tanto su propuesta limita la capacidad de ofrecer servicios esenciales como educación salud seguridad protección social o políticas de reactivación económica

o empleo señor alonso al aprobarse el estatuto

se novaron se novaron señor alonso y se contempló también la cláusula de reserva y yo creo que hacen una interpretación de los derechos históricos provincialista no foralista por otra parte tampoco comparto señor alonso su

su planteamiento de debilitamiento de las políticas públicas a lo que ha hecho referencia también en su intervención yo creo que una sociedad más injusta es la que se derivaría de esa política que usted plantea

da la impresión con esta filosofía política de que su centro es el mercado

adostasunaren alde egindako ahalegina eta erakutsitako konpromisoa biziki eskertzen dugu ante las dudas que alguien parece tener

y constancia no nos vamos a dejar arrastrar por la tensión política permanente el gobierno vasco va a aplicar la constancia

para seguir preservando un marco de entendimiento y colaboración serenidad y constancia para el cumplimiento de los compromisos va a seguir siendo la actitud de nuestro gobierno

o lo que estimen pero desde luego yo manifiesto lo que es

de lo que tenemos por delante por hacer y la serenidad y la constancia que aplicaremos para el cumplimiento de los compromisos termino reconociendo una realidad

lo he dicho por la mañana y lo reitero tenemos problemas que resolver y necesidades que atender ahora bien tengo plena confianza en nuestras capacidades como país

hoy tenemos un país asentado en valores y autogobernado que preserva su patrimonio institucional y social en un mundo global y en un entorno complejo

y con visión de futuro competitivo y ambicioso la sociedad vasca a través de sus instituciones de sus empresas de sus profesionales de sus asociaciones

y esta década es el mejor ejemplo de la resiliencia vasca euskadi es el escudo de vascas y vascos

la incertidumbre y la inestabilidad del entorno euskadi avanza estamos dando pasos juntos para afrontar los retos y transformaciones que se nos plantean en el escenario global euskadi es nuestro escudo y nuestro proyecto compartido

muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes señorías

no le estábamos hablando de ese tema nosotros pensábamos que tenía tantas cosas que hacer que iba a seguir trabajando la explicación ha sido extraña y ambigua como todas las explicaciones

ha citado algunos pero son mucho más profundos se lo expliqué la vez pasada yo no soy nacionalista

sí soy humanista y podemos compartir la visión desde el humanismo cristiano pero somos liberales claro

si la persona es el centro del objetivo y el centro de la acción política la personas tiene que poder actuar

entonces qué ocurre en el país vasco la persona tendrá libertad para actuar hombre si no es del pnv como dice usted

que tú quieres invertir en el país vasco puedes venir a invertir en el país vasco ya desde el pnv te indicarán con qué persona tienes que ir para que la inversión sea más fácil sí

por qué ponen ustedes barreras obsesiones de control quieren controlarlo todo por qué no abren por qué no dejan que la gente pueda efectivamente tener más iniciativa

por qué no vamos en esa tendencia y por qué no reformamos en esa dirección eso es lo que quiere el partido popular a usted se le hace muy raro que una persona que no es de izquierdas en el país vasco no sea del pnv pues hay gente así

no les dice nada de que se autoexcluyen ya los ve fuera solo nos lo dice a nosotros

en el país vasco y que quiere una sociedad abierta y una sociedad liberal y nosotros hemos permanentemente intentado buscar acuerdos con ustedes para

tenemos muy poco éxito en eso es verdad que favorecimos la fiscalidad de nuestras empresas para que no tuviera una desventaja competitiva pero ahora cuando intentamos

chocamos contra un muro hemos chocado contra un muro y esto es lo que hay no quieren ustedes ya hacer esa política no me extraña han cambiado de socios en madrid apoyaron con entusiasmo un presupuesto de psoe y podemos que es que nosotros pues no compartimos son otras políticas

hoy me ha parecido coherente por su parte que

y terminamos la legislatura suplicando al de podemos oye diciendo al de podemos

qué cosas eso sí que es una innovación y es una evolución

porque empezamos de una manera y ahora hemos terminado de otra

porque lo que tiene un miedo cerval el pnv esa es alianza de la que hablaba el señor egibar de

socialista de la que nosotros estamos de aseguro autoexcluidos no nos vamos a meternos jamás en la operación de ese tipo

no sé llama usted la derecha española estuvo en contra del estatuto dice usted

ganó la elecciones un partido que se llamaba unión de centro democrático y fíjese si hubiera sumado sus votos a los de alianza popular tenía mayoría absoluta

decidió que no se podía construir un acuerdo de esa manera con una mayoría así sino que tenía que hacer un acuerdo con el partido socialista con el partido comunista de españa que tenía que hacer un acuerdo con los partidos nacionalistas en la cámara para crear algo que estuviera por encima y fuera más grande eso es lo que hicieron eso es lo que dio lugar a la constitución que ustedes

la redacción de la disposición adicional primera que va a ser piedra de querella

en la comisión sí luego hubo una instrucción

ahora ustedes están entusiasmados con la disposición adicional primera pero no la votaron de hecho dijeron que se abstenían en la constitución porque no les gustaba cómo había quedado y ahora descubrimos que los derechos históricos ha dicho usted ya no son de los territorios forales les va a quitar usted el concierto económico a las provincias

entonces los papeles que ustedes están preparando y que quieren liquidar

del país vasco e incluso su propia crítica a la propuesta que hemos presentados para mejorar la financiación de las diputaciones porque lleva mucho tiempo haciéndose cargo de un gasto social que no deja de crecer

y claro que queremos que haya un modelo más descentralizado en el país vasco

usted lo que quiere es arramplar con todas las competencias y hacer un centralismo invivible dentro del país vasco y arrebatarle también aquello que es suyo y que nadie les ha quito

provincias sí son de los territorios forales álava bizkaia y gipuzkoa

no se los puede quitar usted no se los puede quitar no puede invocar al pueblo vasco para arrebatarles lo que es suyo y nosotros intentaremos que no sea así

de expertos donde hay un experto que es más experto que los demás porque es político en activo y que es el que hace de relator que me parece muy bien y que presentará su texto

efectivamente de la liquidación de los derechos históricos de los territorios forales

concierto político pero se lo diré con claridad aquí no hay más concierto político que el estatuto de gernika

usted puede hacer un estatuto de autonomía pero no hay más camino para concertar políticamente que el del estatuto de autonomía porque eso es respetar la constitución y no hay atajos

usted tiene la responsabilidad de evitar durante estos años

en madrid yo no sé si sabe lo que usted hace y yo no digo que usted no haga cosas me ha leído la agenda de julio

yo no digo que no esté en todos esos problemas y todos los planes

y eso es lo que yo le pido que haga que no nos lleve una bronca que no necesitamos hacer ese camino

me dice usted tiene diferencias dentro de su partido tengo criterio y lo defiendo

porque uno quiere ampliar la base y el otro ha prometido solemnemente a los de este lado que la propuesta que se haga será respetuosa con las bases que aprobaron que era básicamente el derecho a la autodeterminación entonces esta gente

con coherencia y ustedes actúan con divergencia pero en la misma sesión parlamentaria también podía hacerse en días distintos pero en la misma sesión parlamentaria por tanto

es que cuide esas cosas y que mantenga usted su fama de que era un hombre mesurado que no iba a lanzarse a cosas raras fíjate nosotros al final eso fue duro tuvimos que autoexcluir a ibarretxe en su día

pero no se autoexcluye a usted de la convivencia que tenemos y nos garantiza la constitución el equilibrio

sería muy negativo para todos no sé qué vamos a hacer voy a tener que reunirme con el señor lander martínez a ver si llegamos a un acuerdo porque por lo visto los presupuestos son diseñados para podemos y el pp y usted se ha metido en un vericueto

yo puse mis condiciones ya no hablo del respeto que se nos tiene que se nos tiene

respeto pero primero fue el pp y con el pp se aprobó la renovación del concierto económico usted se ha quejado muy amargamente de los gobiernos del pp pero se aprobó esto y se resolvió lo del cupo que era muy difícil

y aprobamos los presupuestos oiga es que es lo que ha sacado esta legislatura eso es lo que ha sacado esta legislatura lo más importante desde el punto de vista político luego fue con eh bildu el año pasado hicieron una escenita en los medios de comunicación

y este año no parece que lo quieran intentar y ahora le toca al señor martínez señor martínez mucha suerte

verdaderamente esto a mí me parece sorprendente pero esta ha sido la estrategia cada año le tocaba a uno a mí al principio luego autoexcluir luego eh bildu

mucha suerte y adelante por euskadi gracias eskerrik asko alonso jauna

ha venido a esta cámara hoy con la intención de decirles que tenemos intención de aprovechar el tiempo que nos queda de legislatura para resolver

y no nos van a encontrar en revolver ni en enredar por lo tanto nuestro interés máximo es cumplir ese programa de gobierno que no es otro que el programa que va a solventar las preocupaciones y los problemas que tiene la gente

que son el empleo la calidad del empleo la calidad de los salarios la falta de igualdad de las mujeres y la calidad y la modernización de nuestros servicios públicos en definitiva preparar el país para los retos lo que me ha sorprendido es que en este umbral en el que estamos de un nuevo mundo de una nueva era que se va a revolucionar hasta nuestra vida más íntima algunos partidos y algunos grupos la quieran construir con los ladrillos del siglo diecinueve señor lehendakari sabe de nuestra clara voluntad política para acordar la reforma y la modernización del autogobierno preguntaba usted cuál era la diferencia entre el concierto político y el concierto económico se lo he explicado

es una propuesta confederal yo creo que compartimos

y por lo tanto yo lo que le invito es a que nos sumemos en una estrategia conjunta para lograr

perder el tiempo y haber perdido el tiempo en la ponencia y si euskadi es hoy lo que es es porque

socialistas siempre hemos estados en construir país en hacer acuerdos

lo que es la euskadi de hoy y daba igual que estuviéramos en el gobierno o en la oposición y daba igual quién gobernara compartimos aquí en esta cámara la construcción de la ertzaintza del ente público

de la escuela pública vasca lo que hace el autogobierno vasco y lo que hace que nuestros ciudadanos vivan mejor el compromiso socialista ha sido siempre el mismo

así conseguimos pactar el estatuto de autonomía y así hemos construido la euskadi social que hoy disfrutamos y en todos esos acuerdos hemos estado los socialistas

hablar de la situación política y de la gobernabilidad en españa

o no elecciones siempre y en este mismo pleno en esta misma sesión el señor lehendakari el señor alonso y algunos otros portavoces han hablado de lo que piensan de la gobernabilidad de españa y yo también igual a otros les da igual quién gobierne en españa pero desde luego a mí no

yo no quiero interrumpir la interesante disputa que tienen con euskal herria bildu pero usted que le reprocha a bildu que siga a pies juntillas a un sindicato recordarle que ese sindicato en mil novecientos noventa y siete decretó

y un año después se firmaba la defunción del estatuto en estella nosotros nos ocupamos de que aquello no ocurriera rescatamos el estatuto y rescatamos el diálogo entre diferentes reconózcame que estamos mucho mejor ahora afortunadamente aunque verdaderamente si españa

que el pnv pide el voto para irse de españa y yo creo que se lo van a agradecer todos los ciudadanos

y señor alonso que no está pero bueno me dirijo a los representantes del partido popular y espero que se lo transmitan los socialistas estamos en la defensa del estatuto de gernika y en la reforma del estatuto para su modernización

que sea útil a los ciudadanos vascos y defendemos el estatuto y defendemos la constitución y el estatuto es parte de la constitución y lo que me parece una indecencia es que ustedes que han sufrido las trincheras como nosotros vuelvan otra vez a construir trincheras en este país

de ser constitucionalistas de la defensa de la constitución yo pensaba de verdad

que no lo han hecho y les voy a exigir el máximo respeto a un partido que votó sí a la constitución sí al estatuto de autonomía y sí a los grandes pactos que han construido la euskadi de hoy cosa que ustedes y su partido

han salido los socialistas en su defensa no lo mismo que ustedes no han hecho lo mismo

probando de su propia medicina lamentablemente pero yo lo que les quiero decir es que hagan política defiendan sus ideas discrepen

pero no utilicen el dolor de las víctimas todos hemos sido víctimas ustedes y nosotros pero no nos arrogamos la voz de ninguna víctima porque las víctimas son muy plurales así que hagan política no resuciten a eta porque afortunadamente la vencimos y

para no interesarle españa le ha dedicado un buen rato a españa en su discurso bakarrik hiru gauza esango ditut usted conoce muy bien de cerca

sobre cantidad de cuestiones concretas en este parlamento lo hacemos incluso a costa de que nos insulten en el resto de españa no nos importa nos importan los acuerdos pero verdaderamente si el año pasado no se cerraron los acuerdos presupuestarios con ustedes fue porque ustedes se mantuvieron en las trece en las mismas posiciones desde el principio principio sin moverse en absoluto y eso son tics absolutamente del pasado

parece que el gen de desacuerdo también anida en euskadi no solo

y en autogobierno pues seguramente podemos coincidir en muchas cosas estoy segura y lo hemos tratado en la ponencia en multitud de ocasiones pero no nos van a encontrar nunca

en la ruptura de la legalidad en la quiebra de la pluralidad o en la categorización de los ciudadanos según su identidad

que estamos deseando que hagan una declaración sobre un principio ético fundamental que es que nunca se debió matar ni secuestrar ni extorsionar ni en nombre de una idea política ni por una razón de estado todos los demás estamos esperando a que hagan ustedes esa declaración porque eso sí que sería

y estamos pendientes queda un año todavía de legislatura así que cuando ustedes deseen estaremos dispuestos y señor martínez eso sí sería histórico porque no hay que abusar

que ustedes a veces lo hacen y lo olvidan porque hasta que ustedes han llegado al parlamento

muchas cuestiones muy importantes que como les comentaba al principio han alumbrado la euskadi de hoy

firmó con eh bildu sobre la ley para estudiar el euskera y usted lo tildó de acuerdo entre diferentes y de histórico acuerdo entre diferentes bueno a mí me parece especialmente exagerado y sobre todo considero que da alas a una izquierda abertzale que justo acuerdo que fue histórico para este país en relación al euskera que fue la ley del ochenta y dos la izquierda abertzale no se mojó y tenía escaños en este parlamento no se implicó en aquella ley y aquella ley

en la ley de la escuela pública vasca ha permitido que hoy tengamos

y ha permitido que usted o mis hijos por ejemplo hayan podido estudiar en euskera en la escuela eso sí que es histórico eso sí que es un compromiso y eso fue

pero hombre yo le daría una pensada señor martínez señores de elkarrekin podemos

en los avances con este país y que ahora intenta responder ante su propia historia

de impedir que se vaya por el barranco usted tendrá que explicar para qué están utilizando los escaños que la ciudadanía vasca les otorgó en las últimas

porque yo no voy a hacer oposición a la izquierda pero realmente ustedes empezaron en este parlamento negando las izquierdas y las derechas luego se autocalificaron como la izquierda vasca ahora dicen ser la izquierda

vasca y útil el partido socialista de euskadi yo desde luego les doy la bienvenida a que vengan a hacer lo que nosotros

a arriesgarse y a mojarse y a apoyar los presupuestos fruto de una negociación por supuesto entre su grupo y el gobierno muchísimas gracias eskerrik asko mendia

ha repetido usted una frase varias veces en su intervención realismo y responsabilidad bueno desde elkarrekin podemos creemos que realismo y responsabilidad precisamente es lo que hay que tener

y me gustará darle algunos datos que evidencian que sí que hay más desigualdad de la que usted reconoce y que el sistema de protección es mucho menos efectivo de lo que usted nos quiere vender

en un ochenta y tres coma siete por ciento las familias que no pueden cubrir sus gastos básicos

se traduce por ejemplo en no poder poner la calefacción en invierno

de cada cien vecinas y vecinos de este país ocho tienen problemas graves de alimentación o no pueden hacer frente a los gastos de la vuelta al cole de sus hijas y de sus hijos hablamos de más de veinte mil personas en dos mil dieciséis hay cada vez más personas que aun necesitándolo están

y cada vez más personas que aun estando en los sistemas de lucha contra la pobreza siguen siendo pobres

realismo y responsabilidad es reconocer la evidencia que la brecha de las dos velocidades de euskadi siga ampliándose

incremento de la desigualdad y esta desigualdad

elkarrekin podemos lideró la iniciativa para acabar con la brecha salarial que se acordó en este parlamento

y publicó una estrategia pero sin la participación de sindicatos sin la participación del movimiento feminista y sin presupuesto

del gobierno vasco por resolver la precariedad y la brecha empezando por su propia casa

porque ha dicho usted que la lucha contra la precariedad no la puede resolver únicamente el gobierno yo creo que

sí puede cuatro de cada diez trabajadores de servicios públicos son temporales

en educación entre el treinta por ciento y el sesenta y cinco por ciento según sectores

más de treinta por ciento y la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos se mantiene por encima del catorce por ciento creo que aquí hay un campo de sobra

su compromiso contra la precariedad en los sectores que sí son responsables de su gobierno es decir no vale solo que nos compre los retos y los temas pero que no nos compre las soluciones y que pida nuestro apoyo por el título que ha escrito el libro en una palabra yo creo que es hora

propuestas concretas cuántos recursos van a tener y qué ambición les pone

las miramos y prioridades de los presupuestos pero a mí me preocupa una cosa que es que también se lo ha dicho al partido popular

que si intenta contentar a los dos no va a encontrar a ninguno

próximos meses para darle a usted la oportunidad de demostrar voluntad y realismo vivienda el decreto de vivienda comprometido con este parlamento y con la ciudadanía exige un avance ya en la regulación de los precios del alquiler sigue parado y el reconocimiento del derecho a la vivienda

se comprometieron a presentarla en el último cuatrimestre de dos mil dieciocho un año después todavía no lo han presentado en este parlamento

quieren un trámite exprés para una ley tan importante porque a este paso

entonces si quieren acuerdos porque todavía no han abierto el diálogo con los grupos parlamentarios o a qué están esperando

la ley de cambio climático nuestro nivel de exigencia y de ambición será el que marca la comunidad científica para que las medidas contra el cambio climático sean efectivas es lo que ahora mismo jóvenes de todo el mundo están revindicando en las calles

de lo que habría que hacer en euskadi para cumplir con lo que la ciencia establece como necesario

que su gobierno tiene que recorrer y también voy a hablar pues porque la señora mendia le ha hecho referencia a la ley que presento euskal herria bildu sobre el derecho al euskera al aprendizaje de euskera y

a mí sí me parece histórico un acuerdo el cual se consigue redactar una ley que garantiza la gratuidad del aprendizaje del euskera hasta el ce uno que garantiza que todas las personas

va a poder aprender euskera y va a poder aprender euskera hasta un nivel

el ce uno no voy a entrar mucho en eso porque son muchas horas las que hemos dedicado a discutir este tema pero sí que

pues creo que la señora mendia y yo debemos de vivir en realidades políticas diferentes

elkarrekin podemos ha sabido leer y adelantarse a los retos de la sociedad

en dos mil dieciséis y sabremos poner encima de la mesa las claves necesarias para que nuestro modelo productivo sea ejemplar en cuanto a la lucha contra el cambio climático dignidad en las condiciones de trabajo igualdad entre mujeres y hombres así como innovación tecnológica

nacimos para defender a las personas de las consecuencias de la anterior crisis económica y vamos a asegurarnos de que en esta crisis que viene no se repitan esos dramas sociales queremos proteger a euskadi queremos proteger a sus familias queremos proteger a sus empresas

kontzertu politikoaz ari zarenean zer esaten duzun concierto económico es la garantía de una relación bilateral

hemos acordado en este parlamento un acuerdo en el que planteamos una relación

garantías efectivas para que pueda ser bilateral un acuerdo pactado con el estado y un acuerdo

una cabida y una manera de ser llevado a cabo

respeto su relato pero le pido la posibilidad de que existan otros relatos

la convivencia será que también convivan diferentes relatos y tendremos que avanzar en la convivencia de este país en la convivencia de relatos distintos con los que

aquí textos ha habido muchos si quiere se lo puedo pasar la última vez que le pasé a un dirigente me dijo que había prescrito era

y eran los textos de loiola los textos de loiola

el consenso existe y es bueno si estoy yo y lo demás es división es exclusión esta patrimonialización indebida del consenso

qué falla tiene una mayoría democrática de este parlamento puede tener desde el punto de vista de convivencia según usted porque claro si no está usted

el pnv veintiocho y las demás formaciones políticas la representación que tienen

te aplico el veto aquí qué desarrollo del principio democrático es ese

máxime si estuviera avalada por una consulta habilitante de ahí no surge ninguna obligación democrática para el partido socialista

ese es el tema de fondo porque ya sabemos que dos millónes doscientos mil o tres millónes de vascos nunca van a ser más que cuarenta millónes ya sabemos el asunto es

surge una obligación democrática para negociar un nuevo consenso un nuevo pacto de convivencia

y hay bloqueo hay que desatascar y avanzar y eso lo personaliza el lehendakari y su gobierno y también las instituciones vascas en las que estamos todos en distinto grado

inposizioaren aurrean ante la imposición respuesta con determinación ante el postureo autenticidad

o tuneado también originalidad naturalitatea komodismoa que algunos confunden estabilidad con comodismo no el comodismo es la mezcla entre

entonces estabilidad sí para liderar